serían una de sus prioridades sabemos que tenemos excelentes profesionales y por ello sabemos que se deben cuidar las plantillas

las ofertas públicas de empleo son una herramienta fundamental para reducir la temporalidad

así entre mayo y junio se celebrarán los exámenes de la ope

que incluye prácticamente la totalidad de las categorías profesionales y especialidades médicas

de hecho se han realizado ofertas públicas de empleo en la mayoría de las legislaturas y en algunas más de una lo que hace que a día de hoy el noventa y dos por ciento de su plantilla estructural

la temporalidad y aumentar la calidad de empleo entre las medidas llevadas a la práctica destacaría

efectuada en dos mil dieciséis la modificación de los criterios de contratación temporal llevada a cabo a principios de este año

la revisión y actualización de cada uno de los procedimientos administrativos que conforman las ofertas públicas de empleo efectuada para agilizarlos al máximo y de hecho la última ha finalizado en veinticinco meses el compromiso de convocatoria de ope con carácter bienal la ope dos mil catorce dos mil quince ya finalizada y la ope dos mil dieciséis dos mil diecisiete actualmente en marcha

abarcan como usted ha dicho la totalidad de las categorías profesionales y permitirá estabilizar el empleo del noventa y cinco por ciento de la plantilla

antes de finalizar la legislatura con las vacantes que se puedan generar en los años dieciocho y diecinueve por último

la eliminación de las tasas de reposición para las administraciones públicas nuestro compromiso con el empleo público

insinuando que pueden perjudicar la creación de empresas y el emprendimiento el gobierno vasco apuesta por el desarrollo económico empresarial lo que no está reñido con el empleo público de calidad ambos son necesarios y complementarios también hemos escuchado críticas de los sindicatos no firmantes de la ope en relación también

parecen olvidar que se ofertan todas aquellas que cuentan con las garantías legales no vamos a jugar con la seguridad del empleo de las personas que se presentan buscando estabilidad además las propias cifras de opositores avalan las ope puestas en marcha

es fundamental contar con profesionales competentes y comprometidos que son sin duda nuestra principal fortaleza beti defendatu izan dugu

que ustedes no lo han escuchado mil ochenta euros y a partir de ahí el ipc

nueve y dieciocho euros más al mes y los guardia civiles y policías nacionales esos que van a por ellos

camisetas amarillas en los estadios esos que van a quitar todos esos lazos amarillos en cualquier momento esos ganaran trescientos euros más los que van a por los jóvenes de

eta gero xentimorik ere ez da ikusi no sé de dónde sacan ustedes que este año sí que este año sí lo van a cumplir la comparsa cada vez es más grande tienen de la mano al partido popular en madrid aquí al partido socialista ahora

pero ustedes nos venderán que nos van a salvar de ciudadanos y con upn

y le han vuelto a dar oxígeno y esta es la españa en la que cuatro ministros cantan el himno de la legión

pues a esta españa le han vuelto a dar oxígeno eta partidu popularrari oxigenoa ematea herri hau

subvenciones a entidades culturales actualización del concierto económico y acuerdo del cupo garantía de incremento salarial

continuidad de las inversiones en euskadi subida de las pensiones en los términos aprobados por este parlamento

estos son positivos para la ciudadanía vasca me puede decir dónde está el problema me puede decir cuál es su alternativa la alternativa es fin de legislatura

nuestra alternativa es seguir defendiendo los intereses de euskadi nuestro empeño es que el acuerdo adoptado por este parlamento para garantizar unas pensiones más dignas y sostenibles se cumpla en beneficio de las personas pensionistas que así lo han demandado

muchos acuerdos de este parlamento a terceros nos ha extrañado que tomara la iniciativa de remitir

en medio de las negociaciones presupuestarias y en elkarrekin podemos nos preguntamos

y de ese mismo día en el que se dice que los presupuestos generales del estado son malos para euskadi

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor martínez la pregunta considera adecuado hacer coincidir la petición del cumplimiento íntegro del estatuto con la negociación que se está llevando a cabo en relación con los presupuestos generales del estado

una proposición no de ley en relación a las transferencias pendientes

del presupuesto general del estado que este parlamento haya hecho coincidir esa es una responsabilidad de este parlamento

mire muchas veces en este pleno a usted le hemos escuchado decir que la oposición confundimos

con las decisiones del pnv dicho

un problema de la oposición porque eso significaría que la ciudadanía vasca tiene un gobierno más transparente

de su propio gobierno son las que dejan claras que son ustedes mismos los interesados en jugar a esa ambigüedad esta semana hemos escuchado a su portavoz al señor erkoreka hablar de las negociaciones que llevaba a cabo el partido nacionalista vasco en madrid

señor urkullu valorar y opinar sobre estos pactos semanas atrás sin ir más lejos ayer el propio consejero de economía y hacienda el señor azpiazu

del eustat defendía a capa y espada el acuerdo de las pensiones no sé qué pensará su socio de gobierno que se supone que es tan crítico con este pacto

ustedes hacen estrategias en las que partido y gobierno comparten objetivos a nadie se le escapa

no es una mera coincidencia igual que no es una mera coincidencia que usted se olvidará de enviarle

el acuerdo de este parlamento en el que se decía literalmente que el actual modelo presupuestario del estado ocasiona un grave perjuicio a la ciudadanía vasca o que en ningún caso deberían apoyarse unos presupuestos generales del estado

por encima del umbral de la pobreza le puedo asegurar que el pacto que su partido ha firmado con el pp de los másteres el de la corrupción el de

de recurso a las treinta y cinco horas laborales del profesorado vasco

autoritaria y antisocial no hace que las pensiones vascas estén por encima del umbral de la pobreza ya le digo yo que no que supone una subida de unos quince euros

de mil euros que bienvenida que bienvenida sea esta

para un problema estructural quince euros que no compensan ni la subida de la luz de los últimos meses y que no ha satisfecho a las plataformas de pensionistas de euskadi que piden como mínimo mil ochenta euros

aplaude en público no es bueno para euskadi pero

y no fue casualidad o es qué ese acuerdo no le convenía ni a usted ni a su gobierno ni a su partido

la razón es que no le convenía a sus intereses a pesar de que si le interesaba a la ciudadanía vasca ese acuerdo

hubiera sido el lehendakari de todos los vascos y vascas y no solo el de su partido eso es lo que le interesaba a los pensionistas vascos le interesa a los trabajadores públicos

señor martínez a usted la parecería lógico que yo enviará una carta al presidente del gobierno español remitiéndole un acuerdo de este parlamento diciéndole que el parlamento aprueba

por otra parte ha visto usted alguna negociación de transferencias en paralelo a la negociación de los presupuestos generales del estado en este ejercicio

ha visto usted alguna reunión de la comisión mixta de transferencias

reunión en la que el partido nacionalista vasco haya planteado una negociación de transferencias que corresponde al ámbito institucional en la negociación de los presupuestos generales del estado

salvo que usted insisto crea que esta ha sido la intención del parlamento desde luego la del gobierno no lo ha sido

entre dos gobiernos y no tiene que estar condicionado por la aprobación

una decisión esta que corresponde al ámbito de negociación de los partidos políticos y la mejor prueba de que se trata de dos cuestiones diferenciadas la encontrará usted en usted mismo

y otra diferente para que no se aprueben los presupuestos generales del estado son dos decisiones distintas coincidentes en el tiempo y usted las trata de forma distinta

antes durante o después de la negociación presupuestaria de este año o de cualquier otro año con este gobierno español o con cualquier otro

imagino que no rechazaría ningún traspaso porque coincidiera con la tramitación presupuestaria de un año determinado

y esta está en el programa en el informe de transferencias pendientes y en el acuerdo del doce de abril de este parlamento y todos estos documentos

nada más ser aprobados no hay por tanto ninguna intención de hacer coincidir nada con nada lo que me preocupa como lehendakari es que tras la pretendida oposición a los presupuestos del estado se defiendan posiciones

con la lucha para erradicar la violencia contra las mujeres y en otro orden de cosas señor retortillo hace dos semanas como consejero de turismo

que representaba al gobierno vasco a la diputación foral de álava y el ayuntamiento de vitoria gasteiz para presentar y defender al territorio histórico de álava

edición del international wine tourism conference una de las citas más importante que sobre enoturismo

a celebrarse el año próximo usted el miércoles once de abril y como consejero de turismo comercio y consumo defendió con la ponencia euskadi

la candidatura de euskadi y de álava ante la elección de la organización

el país vasco como destino de referencia en el turismo en lo gastronómico centrándose rioja alavesa y en vitoria gasteiz finalmente la organización del congreso anuncio la decisión de que euskadi y álava serán los responsables en dos mil diecinueve de esa once edición del congreso internacional de enoturismo el international wine tourism conference ha tenido lugar en países europeos como francia croacia o italia habiéndose celebrado en españa concretamente en cataluña en su edición inicial y en dos mil quince por lo que la concelebración de este congreso el próximo año el año que viene en euskadi y en álava aun mayor relevancia usted manifestó entonces en declaraciones a los medios de comunicación su satisfacción por lo que suponía el reconocimiento a la capacidad de álava para albergar y organizar congresos y de las numerosas potencialidades de rioja alavesa

decía usted además de reconocer el prestigio de la calidad de sus vinos a nivel mundial

turísticamente a rioja alavesa beneficiando también a álava y como no a euskadi para que pueda especificarnos esos beneficios consejero desde el grupo socialista le pregunto sobre cómo cree usted que repercutirá en euskadi y el álava

conference en marzo del dos mil diecinueve gracias eskerrik asko

efectivamente es una excelente noticia que vitoria y rioja alavesa hayan sido distinguidas con la oportunidad y la responsabilidad de acoger la once edición del congreso internacional de turismo para marzo del año

en alguna de nuestras ciudades siempre tiene retornos positivos para el país son más pernoctaciones es ocupación de las instalaciones para congresos es incremento de actividad en los servicios auxiliares restauración comercio transportes etcétera la actividad relacionada con el turismo de congresos el turismo se ha convertido en un importante elemento tractor y dinamizador de la industria turística del siglo veintiuno tiene sobre todo un efecto semilla

de eventos en cualquiera de los territorios desde la presentación que se hizo el año pasado a sus

de forma interinstitucional a partir de la colaboración de mi departamento del de fomento de empleo comercio y turismo de la diputación foral de álava así como del área de turismo del ayuntamiento de vitoria gasteiz y de la ruta del vino hemos desarrollado un trabajo callado y conjunto de todos

la candidatura alavesa para la próxima edición de este congreso un congreso que es

y el turismo enológico y que supone un reconocimiento también a la larga tradición enológica y enoturística

con motivo de la celebración de este congreso acudirán a álava los mayores expertos y prescriptores en turismo enológico un área muy importante para nuestros intereses turísticos como país dada la relevancia que la enogastronomia tiene para euskadi como destino

la proyección de rioja alavesa y del conjunto de álava cada uno de esos congresistas tiene la capacidad bien en su trabajo en revistas especializadas bien en agencias de promoción turística bien en el sector de la distribución enológica o bien como operadores especializados en turismo enológico

de las potencialidades que tiene álava en este sector impulsando su atractivo y promoción en la esfera internacional el congreso se organiza a partir de dos días de ponencias sobre

de trescientos profesionales y periodistas especializados procedentes de una treintena de países

como elemento para la creación de negocio reuniendo a proveedores de productos enoturísticos agencias de viajes

en la comercialización del enoturismo así mismo la organización del evento incluye un área de exposición de proveedores de productos enoturísticos donde participaran

agencias de turismo museos del vino hoteles bodegas etcétera además de la parte congresual desarrollaremos también viajes de familiarización por rioja alavesa

para gente y medios de comunicación con un intenso programa de visitas a proveedores

museos restaurantes y bodegas durante muchos años muchas personas agentes empresas e instituciones han trabajado

de excelencia es de ley agradecer hoy también esa labor lograr ahora a partir de un trabajo insisto conjunto de todos que vitoria gasteiz y rioja alavesa acojan el próximo año el congreso nacional de enoturismo pretende ser no solo

sus empresas y sus profesionales sino también una palanca de impulso internacional para aspirar a nuevas metas y retos de expansión de una actividad que hace de álava también
un destino singular estoy convencido de que lo lograremos eskerrik asko

señorías muy buenos días a todos la semana pasada creo

con el agirre lehendakari center y la universidad

para impulsar una cátedra de estudios vascos

es una institución presidida por el lehendakari juan josé ibarretxe que por tanto es con quien se va a impulsar esta cátedra en quebec se ve que la sombra de ibarretxe sigue siendo alargada llega hasta canadá yo no tengo nada que objetar

vasca por el mundo lo que pasa es que a mí me da la impresión de que

la curiosidad y molestia de leer qué dice desde centro que preside según él y esta es la pintoresca teoría que mantiene el desarrollo inclusivo y solidario de euskadi

compartida respeto de la identidad del pueblo vasco narrativa que le tengo que decir que no es compartida porque el pueblo vasco los vascos

distintas en el siglo veintiuno de una manera creciente y que en la única base de la inclusión naturalmente en democracia pues es que todos nos sentimos ciudadanos compartimos unos derechos nos sentimos amparado por ello por tanto

explicar fuera que explicar por el mundo que el vasco es nacionalista y que ser vasco es ser nacionalista y que el nacionalismo porque esta es la fascinante tesis

y cuanto más nacionalista se es más vasco se es y yo entiendo porque lo dijo también creo que felipe gonzález dijo que los expresidentes son todos como jarrones chinos lo dijo también él de sí mismo

a mí que me va a contar de jarrones chinos o a nosotros pero supongo que ustedes también

y que quizás pues pretenden mantener a ibarretxe lo más lejos posible de acá pero

ustedes en vez de difundir la cultura vasca en el exterior lo que hacen es hacer propaganda del nacionalismo vasco y eso no lo podemos aceptar de verdad piense en la pluralidad

ibarretxe el que cuente lo que somos los vascos porque somos mucho más que su estrecha y particular visión sobre identidad y nacionalismo eskerrik asko

cuestión mire la estrategia marco e internacionalización euskadi basque country identifica a quebec como territorio prioritario el mes de octubre fue cuando yo firme un memorándum de entendimiento con el primer ministro de quebec con el señor couillard

las relaciones en los ámbitos culturales lingüísticos patrimoniales educativos y universitarios y la nueva cátedra del instituto etxepare que nada tiene que ver

contribuya al logro de este objetivo el instituto etxepare cuenta con ocho cátedras y la anterior se firmó por ejemplo en el año dos mil quince con la universidad de en el marco de un convenio de colaboración en el que participó también la universidad del país vasco euskal herriko unibertsitatea

en los viajes al exterior a los que como lehendakari he procedido como también lo demuestra el acuerdo educativo

con colombia pero insisto nada tiene que ver por mucho que en la fotografía apareciera conjuntamente también el lehendakari ibarretxe con una cátedra que él pudiera firmar como agirre lehendakari center

ibarretxe mire los lugares que ustedes eligen para promover la cultura vasca en el exterior son siempre aquellos lugares donde puede haber

de quebec en canadá no hay ninguna otra explicación a eso

y a mí lo que me preocupa es que todos los pasos van en esa dirección los pasos que hacen aquí aprobando documentos soberanistas

para defender y difundir esas ideas nacionalistas en el exterior y a mí eso me preocupa y yo le insto a que desde el gobierno vasco no haga eso y no

eventual proceso soberanista en el país vasco ni ponga pistas de aterrizaje a las tesis del señor ibarretxe en el exterior porque

eso y por tanto tenga mucho cuidado con lo que se difunde y yo le pido y mucha atención a que cuando se hable de quiénes somos los vascos en el exterior se cuente que somos
una sociedad plural y avanzada y no se cuente solamente una visión nacionalista de la realidad eskerrik asko alonso jauna

le suena a usted algo mire tomando como punto de partida el memorándum

la creación de una ventana vasca centrada en cultura lengua y patrimonio y a su vez el instituto tuvo conocimiento de que agirre lehendakari center había planteado otro acuerdo de colaboración en materia de innovación social y urbanismo

anteriormente que el lehendakari ibarretxe procede ante esta coincidencia

el gobierno vasco consideró de interés hacer coincidir en un mismo acto la firma de las dos iniciativas la universidad fue quien organizó una doble jornada académica centrada en el ámbito cultural

y en el ámbito de la innovación social con la participación del lehendakari ibarretxe

y esto es generar mayor interés y notoriedad en la presentación de dos iniciativas distintas

un mismo objetivo extender las relaciones culturales y académicas entre quebec y euskadi como secularmente las venimos manteniendo vascos y canadienses

que significa un acuerdo que no genera obligaciones en su cumplimiento y del protocolo general derivarán dos acuerdos distintos uno con el instituto etxepare

y unas actividades diferenciadas cada uno de los dos acuerdos contará también con una gestión y unos compromisos financieros diferenciados

que desde el punto de vista económico animaría al pnv a apoyar los presupuestos poco han tardado en hacerle caso y decía además

tiene por costumbre hacer gala de que ellos no se meten en política pero luego son sus decisiones las que se llevan a la práctica la patronal se lo está llevando crudo la economía en términos macroeconómicos está creciendo pero todos los beneficios que se están generando se están repartiendo

y en forma de beneficios empresariales mientras los sueldos bajan mientras las pensiones mientras los servicios públicos se deterioran este es un crecimiento que realmente no llega a la mayoría y ustedes en vez de hacer un esfuerzo por compensar la situación y el desequilibrio en favor de la mayoría lo que hacen es alinearse siempre de forma incondicional a favor de confebask da igual que digan que son las mujeres las que tienen tendencia a elegir malos empleos

da absolutamente igual nunca un reproche nunca una mala palabra hacia confebask nunca una acción decidida en favor de los intereses de la mayoría trabajadora de este país

en la cual se dice que todos van remando en la misma dirección en el mismo barco pero yo creo que aquí hay una trainera y ese gobierno su gobierno

va marcando el ritmo y la dirección aunque para ello en sus imposiciones a ustedes se le convierta en jarrón chino como decía el señor alonso no ya a los expresidentes

no tener ningún papel en su gobierno recapaciten hagan un esfuerzo en favor de los derechos de la mayoría está bien que las empresas vayan bien pero
lo beneficios hay que compartirlos en forma de salarios y en forma de fiscalidad eskerrik asko casanova jauna

pues no habremos tenido en la legislatura pasada y en esta legislatura discrepancias públicas con confebask el gobierno vasco pues no las habremos tenido cuando hemos reivindicado el incremento de salarios por ejemplo mire tomando la referencia de su primera intervención y quiero decirlo bien claro en esta ocasión

de los departamentos que lo han suscrito en cumplimiento de lo acordado con la estrategia o en la estrategia vasca de empleo dos mil veinte suscrita entre el gobierno vasco y los agentes económicos y sociales de euskadi reconozco y asumo el error y lo hago personalmente de no haber compartido este acuerdo de manera suficiente aun habiendo cumplido el procedimiento y el calendario habitual seguido en el gobierno

por la existencia de una mesa de diálogo tripartito llamado dialogo social tal y como hemos venido demostrando con acuerdos que datan incluso de julio del año dos mil dieciséis y no hay ninguna divergencia respecto a nuestro compromiso con la mesa de diálogo social y mi deseo es que próximamente pueda contar con una norma quela regule

para contrastar para desarrollar para enriquecer y para realizar el seguimiento del mismo y este acuerdo insisto da continuidad a lo que fue el acuerdo

y sus seis ejes de actuación suscrito en julio del año dos mil dieciséis por los agentes económicos y sociales junto con el gobierno y son las propias empresarias y son los empresarios quienes manifiestan la necesidad de contratar

y son quienes identifican las empresarias y los empresarios los perfiles laborales y los profesionales que van a necesitar

y adecuar nuestros programas de formación e inserción laboral para que no quede un único puesto de trabajo sin cubrir y nuestro compromiso es también sí

con los agentes económicos y sociales y con mayor participación del conjunto del gobierno vasco para lo cual es necesaria la implicación de todos akordioa irekia da

bi mila hogei urteari begira y este es un acuerdo insisto abierto

ámbitos de trabajo están abiertos a la colaboración con otras instituciones con otras entidades con los agentes educativos con los agentes sociales y económicos

hace casi un año a iniciativa de elkarrekin podemos llegamos a un acuerdo para poner en marcha medidas para prevenir y atender situaciones de discriminación acoso o violencia hacía niños

legebiltzarreko presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on antes de responder a la pregunta

por la sentencia que conocimos ayer no es no nik sinesten dizut

adicionalmente es compromiso de este departamento y así lo estamos haciendo fortalecer la coordinación interdepartamental en el ámbito de la libertad afectivo sexual familiar y de género y realizar un seguimiento de las acciones que de forma trasversal se realizar

como elemento clave para impulsar la defensa del principio de igualdad la dignidad y los derechos humanos de todas las personas

dando instrucciones o medidas de corta y pega de un plan a otro que no tienen presupuesto suficiente y que no están teniendo el impacto que todas queremos imagino que usted también tendrá en consideración esto

euros mientras que se destinan trece millónes de euros

sabemos que cada día hay profesionales padres madres familiares en el sistema educativo comprometidos con la igualdad y con la coeducación

a este gobierno vasco que va a remolque en políticas de igualdad y diversidad afectivo sexual insistimos en esta afirmación porque está basada en datos está basada en hechos en informes del issei ivei y de berdindu

que nos demuestra cada día que hay esfuerzo de muchas personas pero que no hay ni un solo euro de presupuesto ni un solo presupuesto suficiente

es un fenómeno estructural presente como afirman desde el ararteko en diferentes ámbitos se expresa en el trabajo en la calle en las casas en espacios de ocio y tiempo libre en las redes sociales en la administración pública sí aquí también y en la empresa privada en definitiva atraviesa toda la sociedad

es la manifestación más grave y extrema de esta discriminación y acoso

los centros educativos son espejos de la sociedad están permeados por el sistema de valores

que sustenta la discriminación el acoso y la violencia el niño niña o adolescente que en esta etapa de construcción de identidad presenta conductas que se consideran no heteronormativas

los estereotipos y roles de género que se imponen a cada sexo

está más expuesto a la discriminación al acoso a la violencia de la sociedad en su conjunto del sistema educativo incluido es urgente redoblar esfuerzos y nuevas medidas para prevenir y erradicar esta discriminación

ustedes tienen mucha capacidad y recursos para anunciar medidas a bombo y platillo en envoltorio de regalo pero aquí nosotras no queremos

hablamos de políticas públicas y de presupuestos el miércoles

no nos preocupa lo que nos preocupa y ocupa son evaluaciones institucionales responsables y serias nos preocupa la prevención las soluciones los plazos los presupuestos en resumen las políticas

del guipuzcoano ha presentado insultos de carácter homófobo en el centro educativo basta de copia

para no ir a remolque para prevenir para que no haya transversalidad primero tiene que haber voluntad política y compromiso de los responsables del gobierno

no entendemos que su consejería que su gobierno

las injusticias que sufren todos los niños y niñas y adolescentes eskerrik asko arana andrea uriarte andrea zurea da hitza

superando la cifra del año dos mil dieciséis y teniendo una valoración muy positiva en lo relativo al segundo punto de la enmienda referida el issei ivei en su estudio el maltrato entre iguales en la educación primaria y eso ya incorpora desde el año dos mil doce la perspectiva con relación al acoso por razón de orientación sexual

de cuarto quinto y sexto de primaria y otros cien centros de primero

en lo relativo a los puntos tercero cuarto quinto y sexto debo referirme a las actuaciones que se están desarrollando en el marco de la elaboración del segundo plan para la coeducación y la prevención de la violencia de género partiendo de la evaluación de plan existente para este segundo plan se ha constituido el equipo motor que en una fase previa está elaborando las bases

en lo relativo al punto sexto la inspección de educación tiene establecido en sus protocolos la revisión de todos los procesos en los que realiza sus actuaciones así en el ámbito del acoso escolar

adicionalmente se encuentran en plena vigencia en los últimos dos cursos el protocolo para los centros educativos

o con comportamiento de género no normativo y a sus familias era berean

bultzatzen ari den estatalizazioari ateak zabaltzea da esto no se trata de una mera cuestión sindical o jurídica y ustedes lo saben bien

la competencia para actuar en instancia en materia de conflicto colectivo viene determinada por las previsiones de los artículos

de la jurisdicción social correspondiendo dicha competencia

a un ámbito territorial superior al de una comunidad autónoma beraz uste dut

arratia está enfadada y está enfadada porque consideran igual que consideraría yo considero yo como ciudadano

claro y honesto claro por un lado aunque sea impopular para no prometer lo que no puede cumplir y honesto para que diga la verdad aunque no quede bien evidentemente no le estoy diciendo a usted que tenga esas cualidades evidentemente

pero considero que usted igual que yo pueden tener el cabreo de la ciudadanía cuando ve que en este país la costumbre es anunciar proyectos improvisados

o cuando se firman convenios y acuerdos sin que haya un presupuesto detrás como el señor arriola por ejemplo el consejero arriola nos ha dicho en más de una ocasión en comisión

creo que usted no va por ese camino creo que usted es una persona que sí es clara en sus posicionamientos y por eso considero que es necesario

esta línea cinco de metro el cabreo de la ciudadanía viene porque en dos mil seis se presentó un proyecto se les dijo que se les iba a hacer la línea de metro y sin embargo

se han hecho los proyectos pero sin embargo no hay financiación para las obras

el trayecto parte del trayecto está indefinido se dijo al principio que iba a llegar hasta galdakao luego que iba a llegar al hospital después que a usansolo después que a usansolo no y ahí están

entiendo que cuando se anuncia un proyecto tiene que haber algo detrás tiene que haber financiación tiene que haber plazos y tiene que haber

ir detrás de las instituciones para pedirles el dinero para construir un proyecto que fueron las propias instituciones quienes dijeron que iban a hacer y sin embargo lo que tenemos aquí es eso

de puerta en puerta a preguntar qué hay del proyecto que ustedes nos prometieron eta ez da bere erantzukizuna baizik eta

asmoa duzuen qué intenciones tienen ustedes dentro

estratégico dos mil dieciocho dos mil veintiocho a la hora de incluir o no y en qué plazos esta línea cinco de metro por un lado hablamos de plazos pero también hablamos del trazado de concretar y eso pedimos si se mantendrá la intermodal de sarratu como estaba en el proyecto original si se mantendrá la conexión al hospital que consideramos que es fundamental si se mantendrán paradas para los centros de trabajo

está la cuestión de los plazos y el dinero que van indefectiblemente unidos quién tiene el dinero quién lo va a poner y cómo se priorizan el gasto cómo se priorizan los presupuestos nuestro grupo considera que a la hora de priorizar

de fomentar las inversiones en el transporte privado en detrimento de las inversiones en transporte público y consideramos que esa no es una vía adecuada pero en cualquier caso entendemos que el gobierno vasco evidentemente tiene una responsabilidad y nos gustaría saber
cuál es su opinión en esta cuestión gracias eskerrik asko

egin behar dira y decía que el transporte en definitiva el transporte público tiene que tener una visión integral lo hemos dicho en más de una ocasión y creo que lo compartimos y para ello además tiene que ser multimodal considerar tanto el transporte ferroviario como el viario

lo que puede ser un ferrocarril de larga distancia o de corta distancia metros tranvías los autobuses eléctricos que también hemos debatido en esta cámara otro tipo de autobuses y los servicios que tienen que prestar incluidos aquellos que puedan ser

de personas todo eso lo tenemos que considerar en función de las necesidades que tenemos que atender sin olvidarnos de que los sistemas de pago las tarifas

esa política siempre pensando además es política del gobierno vasco en cuanto a transporte público compartida con las diputaciones forales

el transporte ferroviario que tenemos que ir alimentando con otro tipo

evitando además duplicidades entre medios de transporte que lo único que hacemos es hacernos competencia unos a otros y no dar un buen servicio en ese sentido sí existen un medio de transporte que es ferroviario y otro viario es decir un tren y un autobús que tienen el mismo origen y destino cuando menos

y dar un mejor servicio todos esos aspectos los tenemos que considerar a la hora de diseñar un sistema de transporte tenemos que analizar y lo decía usted en centros de trabajo qué demandas existen actualmente cuáles son las demandas previstas puesto que cada vez que introducimos que ponemos en marcha un nuevo

una demanda que no estaba previamente muy bien calculada hay que analizar ese sistema no solamente para poner en marcha si es un tren si es un tranvía si es un metro si es un autobús

partimos de todas esas consideraciones para poner en marcha cualquier sistema de transporte o las deberíamos tener muy en cuenta al menos para poderlo hacer de una manera efectiva

las tenemos en cuenta evidentemente pero dónde estamos hoy que es lo que usted me preguntaba dónde estamos en estos momentos respecto a la línea cinco de metro bueno tramitados y aprobados ya los estudios informativos y la declaración de impacto ambiental de dos tramos

galdakao centro y el siguiente denominado también en el estudio informativo galdakao centro usansolo las resoluciones de ambos estudios son de veinte de abril de dos mil quince boletín el

el que llega hasta usansolo de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis y boletín diez de octubre del dos mil dieciséis ahora bien en esta última resolución en la que corresponde

cuando se aprueba el estudio informativo y se analiza qué es lo que dice ese estudio informativo

claramente estudio informativo y declaración de impacto ambiental teniendo en cuenta el origen y destino de las personas y poblaciones que a las que se atiende desde el hospital

para una conexión directa de la red ferroviaria del tramo durango bilbao correspondiente a la línea bilbao donostia a su paso por el municipio de usansolo

de manera conjunta con las conexiones ferroviarias del área metropolitana de bilbao buscando así una optimización de las redes existentes

en el segundo caso en el estudio informativo del tramo galdakao centro usansolo solamente haya quedado un tramo aprobado y hospital usansolo queda vamos a decir suspendido en este momento no está aprobado hasta elaborar ese estudio de alternativas que se ha solicitado en estos momentos está concluyendo el estudio y prevemos tenerlo y aprobarlo a la mayor

sin embargo los tramos ya aprobados el tramo que en el proyecto constructivo se denomina sarratu galdakao centro y el de galdakao centro hasta el hospital

tienen ya proyecto constructivo finalizado estamos pendientes de una última revisión y nos falta la aprobación por parte del gobierno pero los proyectos constructivos en ambos están preparados

proyectos constructivos también finalizados y nos queda el estudio de alternativas entre el hospital y usansolo para analizar cuál es la mejor solución saben ustedes también porque lo dije en esta cámara hace muy poquito tiempo cuáles son las inversiones que se están previendo y los proyectos en los que estamos trabajando

suponer alrededor de doscientos setenta millónes de euros por tanto es importante algo a lo que estábamos haciendo referencia lo que usted hacía referencia cuál va a ser la financiación y hacer una planificación real de cómo podemos asumir esa financiación teniendo en cuenta que desde

sin acabar de financiar y las instituciones tanto diputación foral como gobierno vasco tenemos que hacer una previsión realista por tanto creo que claridad y transparencia es lo que vamos a llevar por delante y lo que estamos tratando además de hacer en las reuniones que se están manteniendo

afectados por la línea cuatro como los de la línea cinco y claridad y transparencia es lo que recoge el programa de gobierno de esta presente legislatura que establece compromiso de continuidad de los estudios necesarios para poner en marcha las líneas cuatro y la línea cinco

punto por punto no voy a reproducir por tanto todas aquellas inversiones pero sí decirles dónde estamos en la actualidad y como usted bien decía la reflexión integral de cómo tiene que ser el transporte en este caso en el territorio de bizkaia afectando a municipio de bilbao sí pero también

el entorno cercano se ha de hacer en la autoridad en la movilidad de bizkaia se está realizando ya esa reflexión estratégica y sabe tener esa visión

integral de cómo respondemos mejor a las necesidades de ciudadanos y ciudadanas cómo nos complementamos de la mejor manera posible con todos los medios de transporte existentes

de la mejor manera posible siempre siendo claros siendo realistas en plazos y no llevándonos a engaño

no tenemos ni los estudios ni tenemos la parte presupuestaria el compromiso es terminar toda la parte de estudios analizar los presupuestos necesarios y hacer una planificación

hacerlo con una visión integral y multimodal y que además hay evitar duplicidades lo comparto pero ese análisis se tenía que haber hecho hace doce años

antes de anunciar una línea de metro había que ver cómo integrarla con el resto de transporte entonces usted compartirá también conmigo la siguiente reflexión y es

sin haber hecho nada sin que haya nada detrás y pasan doce años la gente se cabrea

qué hay que tener una política de transporte claro también es cierto que hay que tener que hay que hacer que esa política se planifique y ahí es donde voy la planificación de unas infraestructuras de transporte usted lo sabe mejor que yo porque son lo suficientemente caras y en este caso así lo es no se puede hacer

está en marcha entiendo que está en marcha la elaboración del plan estratégico dos mil dieciocho dos mil veintiocho de la autoridad movilidad de bizkaia y ahí es en donde yo quería ir evidentemente hay que

eso es cierto pero también es verdad que se puede ir trabajando en la cuestión de los plazos y de la financiación y que se puede cerrar qué se necesita para eso un acuerdo institucional un acuerdo entre las instituciones y esas instituciones tienen que ir de la mano y también tienen que tener una visión conjunta de país y una visión conjunta de qué tiene que ser el transporte yo he dicho en primera intervención tiene que ir antes el transporte público que el transporte privado

es la autopista de pago que va vacía que va a tener un presupuesto de doscientos millónes de euros y sin embargo no vemos esa misma prioridad para una infraestructura como la línea cinco de metro y también la línea cuatro

gente demandándolo usted lo ha admitido también tiene gente demandándolo y sin embargo no tiene esa misma prioridad

y en los acuerdos en los diálogos en las negociaciones que establezcan entre las distintas instituciones y vuelvo a decir ayuntamiento diputación gobierno vasco tiene que quedar claro que la prioridad tiene que ser el transporte público evidentemente ustedes no le pueden hacer en los presupuestos en la diputación de bizkaia no lo pueden hacer

pero ustedes que son los que en las diferentes infraestructuras más voluntad ponen son la institución que más dificultades financieras posiblemente tienen

entonces de esta interpelación sí me gustaría que quedase algún tipo de compromiso de impulsar ese acuerdo institucional

entiendo que debería de ser más fácil y a eso le instamos a que tenga un acuerdo a que consiga un acuerdo a que plasme en el plan estratégico unos plazos definidos y por lo menos puedan ir a galdakao a basauri

cuándo van a empezar las obras cuándo van a terminar quién va a poner el dinero y cuánto dinero va a poner con una previsión realista que como he dicho al principio sea clara y honesta

y por eso le hago esta interpelación y le hago esta invitación gracias

señor becerra solamente recordarle que hay ya dos instrumentos de planificación aprobados que quizá no sean suficientes pero existen

bueno existe una planificación que probablemente habrá que mejorar habrá que complementar han surgido nuevas necesidades y lo tendremos que actualizar en todo ese plan estratégico

comparto con usted que efectivamente es ahí donde lo tenemos que hacer y se lo decía también en mi primera intervención no solamente establecer cuáles van a ser

las infraestructuras que tenemos que diseñar porque en algunos casos además hará falta alguna carretera o mejorar introducir algo nuevo en sistemas ferroviarios hay que definir cómo vamos a llegar a esa población que necesita ser atendida y que actualmente no esté atendida de forma adecuada si hay que poner en marcha una nueva infraestructura hay que planificar

en tiempo y además es decir en plazos y en financiación y todo eso lo tenemos que hacer de forma conjunta y no solo eso yo le quería añadir lo que le he dicho en la primera intervención también en aquellos lugares en los que ya existe un transporte público diario

o se ha puesto ya en funcionamiento una línea de transporte ferroviario también habrá que hacer las mejoras pertinentes para llegar a ser más eficientes llegar a más personas y dar un mejor servicio todo eso lo tenemos que tratar en la autoridad

de la movilidad de bizkaia y efectivamente nuestra voluntad es

qué líneas qué servicios sino efectivamente terminar los proyectos que nos van a poder decir en qué forma vamos a llegar dónde están las estaciones cómo vamos a atender sino establecer la financiación necesaria y cómo vamos a atender esa financiación

instituciones correspondientes para como se ha hecho en el resto de las líneas lo podamos poner en marcha a la mayor brevedad pero siendo conscientes y realistas que son proyectos importantes que son proyectos muy costosos y que requiere un financiación muy importante

tenemos las líneas uno dos y tres del metro de bilbao sin la financiación que se consiguió para ponerlas en funcionamiento luego esos plazos realistas creo que tenemos que asumirlos establecerlos y desde luego

plan estratégico que estamos poniendo en funcionamiento que se está tratando de elaborar nos sirva para que en el futuro también seamos conscientes de las limitaciones en el momento de

poderlas atender siendo realistas y transparentes esa es nuestra voluntad y así vamos a trabajarlo desde luego en el territorio

sino en todo el territorio de la comunidad creo que se hizo también cuando se puso en funcionamiento el tranvía en gasteiz

a pesar de haberse retirado el ere que se presentó en su momento seguimos teniendo un riesgo

respecto a la viabilidad del grupo dónde hay que poner el acento para garantizar la viabilidad del grupo gracias eskerrik asko becerra jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

un mes creo recordar el conjunto del sector del acero está sufriendo mucho a lo largo de esta crisis y no parece estar saliendo de ella

de los tubos desde luego está sufriendo bastante al exceso de capacidad instalado a los precios en estos momentos que se han visto reducidos como consecuencia

reducción drástica de los contratos y además si le añadimos que en el caso del estado español en su conjunto y afecta especialmente a euskadi los precios de la energía son mucho más costosos y además el precio de la chatarra ha subido muchísimo bueno pues nos encontramos casi en la tormenta perfecta qué es lo que ocurre

a repuntar en este caso que nos toca bueno pues en productos tubulares y en el conjunto de tubos reunidos no lo digo yo

es necesario abordar una serie de actuaciones para mejorar la competitividad para mejorar la eficiencia para ser realmente

se ha presentado un plan y bueno en este momento las actuaciones puestas en marcha no han sido suficientes hay que abordar más se planteó un ere realmente

no lo voy a calificar se presentó un ere que se ha retirado yo creo que la voluntad de acuerdo en este momento existe y lo que tenemos que hacer todos es trabajar

para conseguir que tanto empresa y trabajadores se sienten en la misma mesa con voluntad de acuerdo y de conseguir que esa empresa sea competitiva y el gobierno vasco está para ayudar y para conseguir que eso

está en que en esa mesa que se vayan a sentar con buena voluntad y de buena fe se pueda conseguir ese acuerdo para ser competitivos pero no es el gobierno quien tiene que definir cuáles son las actuaciones creo que tanto los trabajadores de esas empresas como la propia dirección

injusto y salvaje porque siendo cierto lo que dice usted de que todas las empresas del acero tienen dificultades y también las tuberas

o un ere para mejorar la competitividad sobre la base de dañar las condiciones laborales en algunos casos puede ser necesario pero no en este

uno la actitud de los propietarios y accionistas y usted lo sabe porque usted ha

que se repartieron los dividendos indiscriminadamente

y a través de operaciones de ingeniería financiera han dejado un agujero de doscientos diez millónes de euros entonces los accionistas

el segundo factor diferenciador de tubos reunidos es la actual dirección

el llamado plan transforma trescientos sesenta todos sabemos que cuando uno da trescientos sesenta grados se queda donde estaba y es lo que ha sucedido el plan transforma trescientos sesenta fue a recortar costes despidiendo contratas y haciendo ciertas actuaciones que han llevado a la empresa a estar todavía peor

las actuaciones ligadas al plan transforma trescientos sesenta dentro de ese grupo directivo hay que destacar

la figura del presidente ejecutivo con una actitud que tengo que calificar de impropia

provocando a trabajadores para hacer de un conflicto laboral un conflicto social y eso no es de recibo

uno en una mesa con la plantilla a tratar de llegar a acuerdos entonces tenemos dos factores que son diferenciadores tenemos un tercer factor que es diferenciador

muy fuerte del ochenta por ciento y a medio plazo no a corto plazo pero sí a medio plazo habrá que tomar medidas en ese sentido habrá que buscar la manera de que las dos acerías sean competitivas y sean viables desde el punto de vista financiero que ahora mismo está en duda como ya he dicho pero también desde un punto de vista

y para eso se necesita avanzar a que estas industrias también sean industria cuatro punto cero como las que tenemos en hannover

y sin embargo a día de hoy la propia dirección no lo está permitiendo productos tubulares puede ser una empresa eficiente

productos tubulares puede fabricar lotes pequeños de alta calidad y en nichos de alta especialización y sin embargo les faltan veinte millónes para comprar una máquina que les permitiría ser

por qué no se está permitiendo y por qué todas las ayudas de innovación que ha dado el gobierno vasco que han sido veintiocho ayudas

qué ha sucedido con ese dinero para que a día de hoy no se tenga ni rastro de los resultados eskerrik asko

es cierto que cada empresa es diferente a pesar de estar en el mismo sector y eso nos lleva a decir que a pesar de estar en el mismo sector algunas son competitivas y otras no lo son

y nos ha traído hasta aquí no la actuación únicamente del actual equipo directivo o del actual consejo de administración probablemente muchas decisiones que se han tomado durante muchos años y algunas decisiones que durante la crisis quizás no se han tomado a la velocidad suficiente ni la forma adecuada por tanto

grados llega al mismo sitio también trescientos sesenta grados es un circulo que lo que hace es abarcar todos y cada uno de los puntos de la planta

hay que poner en marcha diferentes planes la empresa en tubos en acería tiene que ser en este caso competitiva extremadamente competitiva

se ha sustentado la actividad económica del país y también lo tiene que seguir haciendo a futuro pero pasa porque haga dos cosas diferentes sí actuar sobre elementos y productos que ya tiene

que ataquen a otros nichos de mercado y que permitan compensar las actuaciones por ahí tiene que ir la actuación y el acuerdo es indispensable un acuerdo en la mesa de negociación

proposamen zehatzak aurkeztu ditugu lanbideren erreformari buruz eta gizarte laguntzen sistemari buruz volvemos hoy al recurrente tema de lanbide y de las ayudas sociales por la inacción absoluta de este gobierno berriro lanbide eta gizarte laguntzen gaiei helduko diegu

ez duelako ezer egin volvemos a plantear hoy señora consejera la interpelación que ya formulamos el pasado doce de junio del dos mil diecisiete berriro

egindako interpelazioa aurkezten dugu entonces preguntábamos a la señora consejera

a retrasar la reforma de lanbide y la reforma de la normativa que regula las ayudas sociales hoy volvemos a reiterar la misma interpelación en esta tribuna y exactamente le preguntamos por los incumplimientos de los compromisos adquiridos

alcanzados en esta cámara en relación a estas materias es decir diez meses después señora consejera junio

este grupo vuelve a presentar la misma interpelación porque no hemos obtenido porque no hemos obtenido respuesta en este parlamento de los compromisos y los acuerdos

que este gobierno ha incumplido los compromisos en esta cámara

señora consejera acuerdo del veintiséis de enero del dos mil diecisiete suscrito por los grupos que apoyan al gobierno

y se instaba al gobierno a elaborar en el plazo de seis meses un plan de reforma de lanbide estamos en julio de dos mil diecisiete y no tenemos constancia de ese plan de reforma de lanbide que por cierto tenía que ser un plan integral viendo las múltiples deficiencias constatadas lanbide acuerdo del veintinueve de junio de dos mil diecisiete a propósito de la interpelación a la que le hacía referencia del doce de junio que derivó en una moción se insta al gobierno vasco también acuerdo suscrito y firmado por los grupos que apoyan al gobierno es decir el pnv y el partido socialista de euskadi

de veintitrés de diciembre para la garantía de ingresos y para la inclusión social en el primer trimestre de este año es cierto que en el calendario legislativo ustedes llevaban el compromiso del primer cuatrimestre

los dos grupos que suscriben que apoyan al gobierno firmaron que el proyecto de ley se remitía a esta cámara en el primer trimestre de dos mil dieciocho es decir tres primeros meses enero febrero marzo estamos a finales de abril y no tenemos constancia en este parlamento de la remisión de ningún proyecto de ley en relación a la modificación

en definitiva a día de hoy no sabemos nada de la reforma de lanbide y de la reforma de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

para fomentar el empleo para

y para también evitar que las personas se cronifiquen en el sistema de ayudas sociales solo vemos atrasos y solo vemos señora consejera falta de liderazgo de este gobierno en una materia

tanto en el debate de investidura tanto en el acuerdo de gobierno

en esta cámara y en sus dos comparecencias que ha tenido

ezer ikusten estamos perdiendo el tiempo para proponer soluciones efectivas a un problema real llevamos seis años en blanco con el gobierno del señor urkullu sin hacer nada en esta materia al principio negaron el problema luego comenzaron a reconocer el problema y ya el principio de esta legislatura nos presentaron

todo lo que tenía que ver con la reforma de lanbide y con el proyecto de ley que van a remitir

pero bueno hoy nos hemos desayunado señora consejera me imagino que usted

en su respuesta cuando tiene hoy que

tanto de los compromisos adquiridos de este gobierno de su propio calendario legislativo del acuerdo en esta cámara de remitir el proyecto de ley en los tres primeros meses usted hoy cuando tiene que responder de estos incumplimientos nos hemos desayunado con la noticia sorprendente para todos por lo menos para este grupo

van a ser los grupos que sustentan al gobierno el grupo pnv el grupo socialistas vascos los que van a presentar la proposición de ley de modificación de la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social

en un asunto primordial estamos hablando de la generación de empleo estamos hablando del primer problema de los ciudadanos vascos estamos hablando de la consolidación de la recuperación económica estamos hablando de lanbide como un instrumento de referencia para la creación de empleo y ustedes

y la trasladan a los grupos que apoyan al gobierno creo señora consejera

claramente que ustedes han incumplido claramente no solo sus compromisos sino los acuerdos de esta cámara y que desde luego no tienen ninguna credibilidad qué credibilidad va a tener un gobierno que en un asunto clave

al principio de la legislatura lo ha presentado como un eje estratégico de la actuación de este gobierno qué

es incapaz de remitir en los plazos establecidos el proyecto de ley para modificar

la ley para la garantía de ingresos y para la inclusión social y ya no digamos la reforma de lanbide

un gobierno y qué confianza pueden tener los ciudadanos vascos podemos tener

cuando ustedes renuncian rehúyen esa responsabilidad y la trasladan a los grupos que apoyan la oposición simplemente señora consejera me parece lamentable ustedes llevaban este compromiso en su calendario legislativo ustedes lo llevaban este compromiso en sus acuerdos de gobierno usted presentó hace un año casi un documento de bases para la mejora de la renta de garantía de ingresos y hoy nos desayunamos

que algunos trabajos estarían iniciados es decir que estas propuestas que usted nos presentó que eran quince propuestas genéricas propuestas que usted

nos dice ahora que se van a trasladar a esta cámara no por un proyecto de ley sino a través de una proposición de ley de los grupos que apoyan al gobierno usted nos está tomando el pelo usted está tomando el pelo a este parlamento cuando usted presenta esto hace un año

los grupos que apoyan al gobierno parece que van a presentar estas propuestas pero esto le parece serio señora consejera esto le parece serio me gustaría que hubiera estado aquí el señor urkullu

absolutamente esencial prioritario en donde tenemos competencia plena exclusiva donde este gobierno puede hacer cosas tenemos lanbide como lo tenemos

el consejero anteriormente que las empresas pasaban de lanbide y que sus hijos estaban continuamente en portales de internet

y ustedes que hacen señora consejera renuncia a su responsabilidad incumplen sus compromisos

yo espero señora consejera pues la verdad es que no espero mucho de este gobierno la verdad es que poco espero de este gobierno

que sí que va a ver una iniciativa en relación a la modificación de la renta de garantía de ingresos pero claro que este gobierno

de elaborar un proyecto de ley y remitirlo

por sus hechos les estamos conociendo pero ya ni como los malos estudiantes

ni se presentan al examen y encima hacen

son incapaces y han sido incapaces de dar la talla en un tema absolutamente

en el tema de lanbide en el tema de las ayudas sociales y desde luego decepcionante eskerrik asko eskerrik asko garrido andrea amaitu zaizu denbora erantzuteko artolazabal andrea zurea da hitza

me ha dedicado una serie de piropos no me queda más remedio que responderle a alguna serie de cuestiones que desde luego no comparto

la utilización que los grupos políticos que sustentan a este gobierno han realizado para la presentación de esa proposición de ley

en la tramitación de otra serie de leyes de importancia tanto o más que la propia que hemos o que es objeto de debate en este momento nuestro trabajo

tenemos la confianza total de este pueblo porque así lo está demostrando elección tras elección a la hora de emitir su voto y hemos cumplido con el calendario legislativo que este gobierno se había

del año la proposición o una propuesta de modificación de la renta de garantía de ingresos

son la reforma de la ley de garantía de ingresos e inclusión social y la reforma de lanbide en euskadi contamos con un instrumento como es el de la renta de garantía de ingresos orientado a prevenir el riesgo de exclusión paliar situaciones de exclusión personal social laboral y facilitar también la inclusión de quienes carecen de los recursos personales sociales o económicos suficientes para el ejercicio efectivo de los derechos sociales de la ciudadanía el quince de diciembre de dos mil dieciséis a través de la proposición no de ley

el parlamento acordó iniciar la modificación de la normativa reguladora con el objeto de optimizar todos los aspectos inherentes

a tales efectos yo mismamente presenté en la comisión parlamentaria de empleo el denominado documento de bases para la mejora de la renta de garantía de ingresos

el objetivo primordial del documento persigue la actualización y mejora del sistema de renta de garantía de ingresos destacando cuatro labores la primera corregir las disfunciones observadas en segundo lugar adaptar el diseño de la prestación al actual contexto socioeconómico

y el conocimiento que le permitan mantenerse en la vanguardia de las políticas sociales en el entorno europeo y es en lo que estamos y es lo que hemos hecho

acordó instar al gobierno vasco a presentar en el primer trimestre del año dos mil dieciocho el proyecto de ley de modificación

al mismo tiempo también se nos daba y se nos decía que teníamos que dar voz a las instituciones agentes y colectivos del tercer sector para que dieran a conocer sus propuestas hemos analizado con detalle las aportaciones que se han realizado en la veintena de comparecencias que han tenido lugar en torno a esta propuesta de modificación

hoy nueve días perdone desde la última comparecencia que se realizó en el parlamento hasta la presentación por parte de los grupos que sustentan al gobierno

de ley y lo hemos hecho simplemente porque teníamos un compromiso con esta cámara de trabajar las aportaciones que se hicieran por parte de los colectivos que algo tenían que decir

de educación de cortesía atendimos todas las iniciativas que se presentaron y la última fue el dieciocho de abril pasado

además se creó un grupo específico en la mesa diálogo civil y también hemos tenido en cuenta los diferentes informes elaborados por el ararteko por todo ello

sus resultados se refleja en la proposición de ley de garantía de ingresos para la inclusión social que se ha presentado esta mañana por los grupos

esta fórmula de tramitación supone una mayor agilidad en los plazos de tramitación de la ley lo que posibilitará su entrada en vigor en el plazo más breve posible para proteger

de la proposición de ley hoy presentada destacamos las prestaciones económicas que contempla el nuevo texto que se denominan renta garantizada para pensionistas y renta de garantía de ingresos

a los gastos asociados a sus necesidades básicas simplificando su tramitación y gestión y que sustituye a la que hasta ahora era el complemento de pensiones

las condiciones para ser incluidas en su ámbito de aplicación

asumiendo lanbide el papel de ofrecer alternativas específicas de carácter ocupacional o laboral antes de superar un tiempo determinado de percepción continuada de la prestación

se establece una fórmula para determinar la cuantía de la prestación compuesta por una cuantía base para todas las unidades de convivencia y un sistema de complementos alineado con el enfoque que el gobierno vasco aplica en otros planes de apoyo a las familias y a la infancia pretendemos aumentar la protección respeto a las hijas e hijos de las familias acogidas a la rgi

se contempla también un nuevo régimen sancionador destacando la corresponsabilidad tanto para las personas beneficiarias de las prestaciones como para aquellas que colaboren de forma deliberada

a los posibles incumplimientos realizados finalmente

que tiene como finalidad la modernización del sistema de atención a las personas usuarias de sus servicios y la incorporación de nuevas tecnologías de la información y comunicación

y beneficiarias de sus prestaciones atendiendo a las especificaciones derivadas de la legislación de la protección de datos para que la entrada en vigor de la ley cuente con un reglamento aplicativos informáticos formación de las personas y una versión de lectura fácil de derechos y obligaciones de las personas beneficiarias planteamos una vacatio legis de seis meses para su desarrollo y para que la entrada

en el texto legislativo presentado también se incluyen y se recogen las ayudas de emergencia social tal y como aparece en la ley de instituciones locales de euskadi

esta cámara el veintiséis de enero de dos mil diecisiete aprobó la proposición no de ley en la que se nos instaba a presentar en el plazo de seis meses un plan de reforma de dicho órgano el trabajo para este plan de reforma se ha hecho dentro del organismo recogiendo todos los trabajos en curso derivados del plan estratégico de lanbide dos mil trece dos mil dieciséis el primer informe fue contrastado en el seno del consejo de administración de lanbide de veinte de noviembre de dos mil diecisiete comisiones obreras ugt y confebask solicitaron al consejo de administración de lanbide el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete la creación de un grupo de trabajo que se ha reunido en diversas ocasiones

un documento de consenso excepto en lo referente a la polivalencia del personal técnico de las oficinas locales de empleo

además de los agentes sociales y sindicales hemos recogido la opinión del tercer sector y hemos comunicado a la mesa de diálogo civil el trabajo realizado

iniciamos un trabajo con los grupos para presentarles el documento elaborado aclarar dudas y recoger aportaciones en el cual su grupo también ha participado el compromiso

al parlamento para su debate en un monográfico de empleo en la comisión de empleo y políticas sociales y en ello estamos en el próximo consejo de gobierno ira a

y el plan de reforma y modernización tiene seis elementos claves mejora de las capacidades institucionales mejora de las funciones de activación de empleo con resultados sostenibles funciones de dirección para regular y coordinar y garantizar la calidad de los servicios mejora de la comprensión de las necesidades de empleadores y empresas

el esfuerzo realizado para la definición de este documento y la participación de todos los agentes ha retrasado un poco la presentación de esta reforma pero los cumplimientos

en esta cámara los hemos llevado a cabo señora garrido hemos impulsado la reforma de la renta de garantía para garantizar que las ayudas sociales lleguen a las personas que más lo necesitan mejorando su eficiencia favoreciendo la inserción y evitando la cronificación

pues señora consejera la verdad es que no doy crédito

como desde luego seguramente las portavoces en materia de asuntos sociales

cómo usted hoy si se presenta una iniciativa en el registro en esta cámara que no ha pasado por la mesa

usted me viene a decir que respeta al parlamento cuando aquí nos presenta como gobierno una iniciativa que han presentado esta mañana registrado dos grupos en el registro en el parlamento vasco y que todavía no ha pasado la mesa que por cierto la semana que viene es el miércoles

pero usted es que me parece absolutamente lamentable y vergonzoso se lo tengo que decir así señora consejera o sea usted ha sido incapaz de cumplir los compromisos adquiridos los acuerdos que han firmado los grupos que apoyan a este gobierno en esta cámara y hoy nos viene a esta tribuna no nos dice la fecha en la que va a presentar un proyecto de ley

y nos viene a anunciar la iniciativa que han presentado los grupos parlamentarios y usted cómo la conoce porque la ha hecho usted no usted cómo la conoce

si el resto de los grupos la conocen el resto de los grupos yo creo señora consejera que menudo

usted hablaba de un proyecto de ley hoy le ha quitado importancia a este proyecto de ley diciendo que no era de los más importantes un proyecto de ley clave en esta legislatura

se acompañan una serie de documentos que son preceptivos que precisamente además hubieran hecho consideraciones muy interesantes y muy valiosas para la tramitación del propio proyecto de ley en esta cámara hay que decir claramente

todos esos informes preceptivos que acompañan a un proyecto de ley o sea ustedes yo creo que es que

no sé ni cómo calificarlo señora consejera o sea usted hoy viene a esta tribuna incumpliendo sus compromisos sus acuerdos

y nos detalla el contenido de la proposición de ley presentada por los grupos que apoyan al gobierno si el compromiso lo tenía usted cómo además

que han cumplido el calendario legislativo pero cómo un gobierno puede cumplir un calendario legislativo cuando tienen que ser los grupos que le apoyan los que le traigan la iniciativa al parlamento porque

de haber traído el proyecto de ley a esta cámara pero cómo me puede decir usted que ha cumplido el calendario legislativo pero cómo me puede decir usted que ha cumplido el calendario legislativo

el acuerdo del pasado veintinueve de junio en el que se instaba al gobierno vasco a presentar en el primer trimestre del dos mil dieciocho el proyecto de ley

cumplido los compromisos ha hecho todo menos cumplir los compromisos lo único que ha hecho aquí

es desgranarnos la iniciativa de dos grupos parlamentarios menos mal también que el señor lehendakari esta mañana

de lo que es el gobierno y de lo que son los grupos parlamentarios bueno poco le ha faltado a este gobierno para a la primera de cambio saltarse esa división escrupulosa que por lo menos el lehendakari pues nos ha explicado esta mañana porque usted vamos se la ha saltado a la primera de cambio bueno pues leeremos el miércoles

iniciativa que ustedes y que usted ya debe de tener que los grupos desde luego todavía no tenemos la estudiaremos y también tomaremos nuestras iniciativas propias pero desde luego me parece señora consejera que su actuación hoy en esta cámara es absolutamente lamentable decepcionante y desde luego que este gobierno no tiene ninguna credibilidad hoy con lo que hemos visto en esta tribuna y con lo que nos hemos

esta mañana en relación a lanbide si lanbide usted no ha presentado ninguna reforma me decía tuvimos una reunión el día antes de navidades

no sabemos nada más de este gobierno por lo tanto ese consenso me parece que también difícil lo va a tener

desde luego señora garrido yo tengo respeto máximo a esta cámara y así siempre lo he manifestado y desde luego no comparto calificativos que hacia las iniciativas que los grupos políticos que sustentan este gobierno o que el propio gobierno realiza

lamentable decepcionante incapaz de cumplir

yo señora garrido creo que existen numerosas formas de tramitar

el gobierno o que los grupos políticos estiman y que creo que una forma de tramitar una ley puede ser perfectamente vía proposición de ley además en este caso teniendo en cuenta la premura

la sociedad vasca nos exige con el objetivo de que se mejore esa ley para proteger de la forma más adecuada a los ciudadanos y ciudadanas de este país y es lo que hemos hecho señora garrido le guste o no le guste este gobierno ha liderado

la tramitación de la ley que va a mejorar la protección va a consolidar el modelo de servicios sociales con el que este país se ha dotado

a beneficiar al conjunto de la sociedad vasca la proposición de ley tiene una serie

una mayor protección a las familias a los menores a las personas refugiadas a las personas con discapacidad también a las afectadas por violencia de género

y una mejor y más sencilla comunicación entre la administración y las personas usuarias somos conscientes de que lanbide es proveedora de servicios

de relaciones de cooperación hemos de conseguir que las personas trabajen mejor y en empleos estables y duraderos y para eso hemos estado trabajando para consolidar un servicio público y un sistema de protección que ayudarán a que euskadi sea un territorio cohesionado y solidario

constituyen una prioridad de euskadi y de la unión europea y no solo a través de medidas de acceso a unos ingresos mínimos sino también mediante otros mecanismos como los orientados a generar un mercado de trabajo inclusivo

con el plan de reforma y modernización de lanbide y la proposición de la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social que hoy se han presentado en esta cámara este país

solidaridad avance económico y desarrollo sostenible y ejemplos de tramitación de la ley vía proposición de ley los hemos tenido en esta cámara durante muchos años un ejemplo la pasada legislatura fue la ley de vivienda en suma

los aspectos de pobreza que viven las personas excluidas para que el acceso al empleo y a una vida digna sean reales conferir derechos sociales a las personas es la mejor forma de prevenir y paliar la pobreza y la exclusión social y es lo que este gobierno con la propuesta

pretende conseguir espero que seamos capaces de conseguir un amplio consenso para esta propuesta que contribuirá a la desaparición de las desigualdades en nuestro país señora garrido

cumplimiento a la propuesta no de ley de garantía de suministros básicos para una vida digna eskerrik asko eskerrik asko

gracias señora presidenta señor martínez tal y como se le indicó en la respuesta escrita sobre esta misma pregunta la proposición no de ley afecta a competencias de diversos departamentos en consecuencia voy a limitarme a responderle

lógicamente a mi departamento le concreto las medidas que hemos llevado a cabo con relación en el establecimiento de indicadores sobre los déficits de materia

un diagnóstico para introducir entre los indicadores contemplados en el inventario de barrios vulnerables uno de deficiencia energética y riesgo de pobreza energética en el parque residencial

generación de un plan específico y con dotación presupuestaria anual para la regeneración de vivienda en cuanto a eficiencia energética priorizando las zonas degradadas económicamente

durante el año diecisiete se han analizado los barrios de situación de vulnerabilidad alta o muy alta y el objetivo es conceder en aquellas zonas cuyos ayuntamientos se comprometan a ello

que se van a iniciar de forma escalonada durante los próximos ejercicios
en función de la disponibilidad presupuestaria eskerrik asko arriola jauna

un informe evaluando las medidas para atender a las personas y a los colectivos que sufren la pobreza energética

del gobierno vasco con las competencias propias del propio gobierno tercero financiar las partidas presupuestarias de las ayudas de emergencia social cuarto

quinto información al consumidor vulnerable y sexto instar al estado a realizar una ley contra la pobreza energética y lo siento en base a los informes que nos

el cumplimiento de las pnl y las preguntas por escrito que hemos ido realizando la verdad es que el sinceramente deficiente en ninguno de los informes se hace referencia

cámara información al consumidor ninguno de los dos informes que ha remitido este gobierno

en la portada de la página web le preguntaremos al señor retortillo sobre eso pero ni siquiera el gobierno es capaz de decir lo que está haciendo

de una forma deficiente a pesar del aumento presupuestario y si no

del presupuesto y respecto al plan de rehabilitación efectivamente usted ha relatado en su pregunta lo mismo que me relató me contestó por escrito a la pregunta que habíamos mencionado pero eso no es un plan específico que es lo que venía

al gobierno y tampoco se hace una planificación exhaustiva de lo que va a ser esos planes de rehabilitación en materia de eficiencia energética para evitar las situaciones de pobreza

en cuenta también por ejemplo criterios de renta criterios por ejemplo efectivamente como

alta o muy alta pero necesitamos una planificación más concreta por parte del gobierno y sobre la normativa

propia del gobierno vasco de euskadi para hacer frente a la pobreza energética nada

le invito a que si como no lo sé si usted lo sabe pues yo estaré encantando de realizar la pregunta al consejero o consejera del ramo y yo creo que la mejor y esta sí que le compete

la respuesta textual durante el año dos mil diecisiete se ha desarrollado un diagnóstico sobre las posibilidades de introducir un indicador relativo a las condiciones de eficiencia energética tras la realización de ese análisis durante el año dos mil dieciocho se va a lograr el análisis de ese indicador

nada de lo que quiere decir es decir se ha hecho un diagnóstico luego ese diagnóstico se convierte en un análisis y ahora en dos mil dieciocho se va a realizar el análisis de ese análisis yo no sé lo que ha estado realizando el gobierno no sé si necesita tanto tiempo para

en dos directivas de la comunidad de la unión europea yo creo que ya es el momento de pasar del ojalá a cumplir los mandatos de este parlamento

desde la oposición a la señora artolazabal no faltamos el respeto solo al parlamento vasco si no cumplimos las propuestas no de ley que entre todos y todas aprobamos sino que la ciudadanía vasca también merece una respuesta mejor parte de este gobierno eskerrik asko

no de ley pero le agradecería que a mí me hablara en la medida de lo posible de lo mío

con relación a mi responsabilidad como consejero de medio ambiente ordenación del territorio y vivienda

objetivos acciones costes y beneficios de un plan de acción

que pueda integrarse en una estrategia de regeneración urbana a nivel de todo euskadi y esta metodología contempla tres fases

a fin de disponer de una base de datos de los edificios ordenada en función de sus características significativas

energética la caracterización energética de este parque residencial

posteriormente intervenciones en esta materia este estudio ofrecerá ya

necesaria para habilitarlos y evitar la situación de pobreza energética y también cuáles serían estas variables

en la mejora energética y sus costes y por otra parte la caracterización económica del plan mediante la evaluación de hasta doce escenarios de intervención sobre el parque residencial

sobre los precios de intervención de forma que conjugando todas estas variables con factores como la duración del plan

en un periodo determinado inversión requerida ahorros económicos energéticos y de emisiones conseguidos demanda previsible de materiales y empleos generados y además sabe usted que estamos actuando de forma específica en una serie de barrios con una

que se ha actualizado y que lo que nos dice es que estos barrios están situados fundamentalmente en la margen izquierda de la ría de bilbao municipios más densos de alto y bajo deba bahía de pasaia zona fronteriza de irún y algunas zonas de

hacer actuaciones integrales de regeneración de barrios en los que también por supuesto

que permitan rehabilitar integralmente zonas que están

con una necesidad evidente de actuación por parte de eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua galdera

gracias señora presidenta señor otero antes de entrar a responderle quiero puntualizar una afirmación que hace usted en la justificación de su pregunta

que lleva su nombre no se pusiera en marcha esto no es cierto y usted lo sabe la paralización de la central tampoco se consiguió aun siendo importante por la lucha del movimiento antinuclear

fue consecuencia de las muchas bombas y de los cinco asesinatos que eta

esa es desgraciadamente la verdad y no es bueno ocultarlo

bien me pregunta usted qué opinión tengo sobre la necesidad de recuperar la cala de basordas donde está construida la estructura de la central nuclear

y sobre esta misma cuestión ya preguntó en su momento a la consejera de desarrollo económico y su grupo ha presentado una proposición no de ley en esta cámara

mire señor otero en este asunto como consejero no es mi función tener opinión mi obligación es aplicar en los asuntos de competencia de mi departamento

que se ha aplicable en cada momento y lo cierto es que a día de hoy no se ha presentado ante el departamento de medio ambiente planificación territorial y vivienda

no hemos tenido que tomar ninguna decisión ni dar ninguna medida hasta el día de hoy eskerrik asko arriola

sobre lo que usted dice que es la verdad lemoiz se paró por muchas cosas evidentemente lo que usted dice también está en medio

que la moratoria nuclear decretada en el ochenta y cuatro tiene mucho que ver con la quiebra o la casi quiebra de las grandes eléctricas y cómo salió el gobierno de españa al rescate

fueron unos atentados cuando la verdad es múltiple

señor otero usted y yo sabemos cuál es la normativa legal

a estos terrenos de la cala de basordas básicamente

el plan territorial sectorial de protección y ordenación del litoral del país vasco

de lemoiz y como usted bien decía se plantean dos alternativas el desmantelamiento y recuperación del estado original de la cala

priorizando aquellas que coadyuven a la recuperación del emplazamiento y en ambos casos efectivamente se requiere un plan especial de ordenación que debe de aprobar el ayuntamiento el ayuntamiento de lemoiz

se nos presenta un proyecto concreto lo estudiaremos lógicamente con toda la atención que este espacio se merece

con relación a lo que se contemple en cuanto a los terrenos y en cuanto a las instalaciones y todo ello en su caso y por supuesto en base exigible en materia de planificación territorial y medio ambiente

por eso creo que me permitirá y le parecerá muy bien que yo le haga caso y siga un orden lógico primero propuestas

después en su caso informes de ordenación del territorio y medio ambiente y lógicamente nadie

en lo que son sus competencias lógicamente no las tenemos y las ejerceremos para ejercerlas

y como consecuencia de las propuestas y los proyectos vendrán los informes eskerrik asko

yo también creo a la mujer violada en sanfermines y desde aquí me sumo a las concentraciones que se estarán produciendo a estas horas eusko jaurlaritzak

aldeko konpromisoa erakutsi du neurri zehatzekin ubera andrea mire señora ubera a parte de sus obsesiones ni el gobierno

tiene ningún modelo de fraude en la empresa que más empleo crea en euskadi si tiene usted conocimiento

con la persona que diga que hemos amortizado su puesto de plantilla estructural en el momento que usted quiera a su entera disposición

pese a que algunos grupos políticos que lo quieren abandonar les moleste en consonancia con el mismo el departamento de salud ha asumido desde el inicio de la legislatura tal y como anunciamos en la presentación de las líneas generales del departamento este compromiso

sus causas su estado y las necesidades de las diferentes organizaciones de servicio con el fin de mejorar la calidad de la contratación yo nunca me he comprometido a decir que puede desaparecer el contrato de acumulación de tareas porque no es posible

a que con carácter se utilice solo para la cobertura de que se producen en las organizaciones y claro que a lo largo de un mes

la misma persona tener dos contratos porque puede haber una baja de una persona de plantilla estructural que sea de una semana y por lo tanto se contrata esa semana y al cabo

he de decirle señora ubera que la eventualidad no se ha convertido en un problema crónico y que no comparto que las cifras que usted da porque no son reales mire me lleva pidiendo toda la legislatura

las cifras de contratación de osakidetza por diversas fórmulas mes a mes y yo se las facilito

desde un ente público del tamaño de osakidetza con la complejidad que tiene y la descentralización administrativa que es menester y disfruta para dar un servicio de calidad

y muchos otros aspectos no somos autocomplacientes de hecho la calidad en el empleo es una de las metas del departamento de salud y de osakidetza

y también a una mayor satisfacción de los trabajadores y a la calidad de la prestación asistencial por eso estamos empeñados horregatik ubera andrea enpleguaren kalitatea hobetzeko

se han impulsado medidas concretas que lejos de promover contratos precarios contribuye a garantizar un empleo público de calidad

una de las administraciones públicas tanto en euskadi como en el resto del estado que con mayor regularidad y desde hace más tiempo ha realizado ofertas públicas de empleo

pero miren nosotros defendemos el criterio de seguridad jurídica especialmente cuando se trata de un número tan importante de plazas

y con el volumen de personas que opositan a ella desde la responsabilidad del gobierno no podemos permitirnos hacer demagogia con cuestiones tan serias como la seguridad del empleo de las miles de personas que se presentan a cada una de las convocatorias

en cualquier caso las ope efectuadas y las que están en ejecución

empleo estable y de calidad cabe resaltar además que dicho empleo tiene una marcada incidencia en la población femenina a modo de resumen le voy a dar los datos

de ofertas públicas de empleo de los sucesivos gobiernos que han gestionado el departamento

una oferta pública de empleo con mil plazas en el año mil novecientos noventa y siete con novecientos tres

en el año dos mil once dos mil cuatrocientos veintidós en dos mil catorce dos mil quince mil catorce plazas en la actual en marcha

a ochenta y seis categorías qué quiere que le diga

y pocas muy pocas las que quieren salir

por algo será no deben ser tan pésimas y precarias las condiciones laborales como usted repite constantemente pero parece que nadie le cree

está ahí los exámenes se van a realizar las próximas semanas cumpliendo los compromisos del gobierno una ope que supone un logro no solo de osakidetza o del departamento de salud sino también de los sindicatos

por el empleo estable llegando a acuerdos organizaciones sindicales que han visto el valor de la oferta realizada y que han sido capaces de llegar a acuerdos y también es un reflejo de aquellas otras organizaciones sindicales que no han firmado y que hablan por sí solas de su compromiso

un acuerdo alcanzado en la mesa sectorial celebrado el pasado veintitrés de junio del dos mil diecisiete y que incluye un compromiso de una nueva oferta pública de empleo con las vacantes del dos mil dieciocho

que me está usted hablando antes un acuerdo que parte de la voluntad de mejorar la calidad del empleo y que recoge el compromiso de osakidetza de que el noventa y cinco por ciento de la plantilla estructural

la plantilla estructural por ley la aprueba una vez al año el gobierno vasco lo tiene usted permanentemente a su disposición un acuerdo que también incluye

a efectos de analizar la factibilidad de convertir determinados puestos temporales

también lo criticara usted otra de las medidas adoptadas ha consistido en impulsar la asignación de nombramientos interinos en vez de nombramientos eventuales donde las circunstancias lo permiten además

como usted ha dicho el nombramiento eventual de carácter estable y flexible cuyas características parece que a usted le preocupan

quizás debería saber que las características de dicho contrato fueron objeto de negociación con las organizaciones sindicales y se acordó con uno de los sindicatos con representación en la mesa sectorial

lortuko duten modukoa y no dejen saco roto le espero con la persona esa que me dice usted

que tiene un inicio y un fin no es una amortización es una finalización de contrato me ha parecido entenderle que le parecía a usted ridículo tres mil trescientos treinta y cinco plazas en una oferta pública de empleo

un veinte por ciento no residentes en esta comunidad

critica usted que los sindicatos negocien bueno pues está usted dividiendo a los sindicatos entre buenos y malos o sea los que le apoyan a usted y los demás para mí no

bienvenidos sean abiertos estamos a llegar a acuerdos con ellos y a acuerdos estamos llegando no con todos con los que les interesan de verdad los problemas de los trabajadores

vamos a ver la calidad y estabilidad del empleo en osakidetza se ha visto reforzada esta legislatura

a través de la oferta pública de empleo y a través del resto de medidas que hemos tomado

necesaria y negociada con las organizaciones sindicales que tuvieron la oportunidad de realizar cuantas estimaciones estimaron oportunas la duración de dicho contrato se establece para un año siendo posible la prórroga y en su caso la consolidación a efectos de plantilla estructural

qué pega le ve usted a que a día de hoy más de un centenar de médicos de familia

en virtud de lo cual han mejorado la estabilidad y calidad de sus empleos se da el caso además de que mire un tercio de esos contratos acredita

incrementa la capacitación lingüística en euskera de los profesionales

conforme a los criterios del vigente plan de euskera de osakidetza que por cierto también es

de las personas usuarias como ya he mencionado a lo largo del pasado año dos mil diecisiete

nombramientos interinos de tal manera que solo el año pasado

nombramientos interinos datos seiscientos setenta y nueve médicos y médicas quinientos sesenta y dos enfermeras y enfermeros

trescientos nueve interinidades en la administración gestión y servicios generales y trescientos sesenta y siete celadores y operarios realidades señora ubera

estable de calidad en la administración pública con unas condiciones francamente buenas señora ubera en la actualidad

estable lejos muy lejos de la precariedad e inestabilidad que pretende usted pregonar

dónde ve usted la precariedad laboral qué plazas se han amortizado

zeintzuk dira amortizatu diren lanpostuak cuando gobernaron ustedes la administración de la diputación foral de gipuzkoa alguna de los ayuntamientos qué empleo han generado

egun on berriro egun on sailburuak pues volvemos a hablar de la ope en osakidetza vemos que

interés en los grupos parlamentarios en este caso señor consejero por algo absolutamente previsible que ha planteado el partido popular y que usted conoce en reiteradas ocasiones como usted bien dice en la ope están convocadas tres mil trescientos treinta y cinco plazas prácticamente en todas las categorías profesionales y especialidades médicas se han presentado noventa y seis mil personas dieciocho mil de fuera

y a parte de las plazas que tienen asignado un perfil lingüístico determinado el euskera se valora como mérito y se valora bastante como mérito hasta un diez por ciento en relación al resto de méritos y hace que el euskera se convierta en un elemento determinante a la hora de acceder a una plaza en osakidetza no sé qué posibilidades tendrán ese veinte por ciento de personas que se han apuntado de fuera

un puesto en esta convocatoria pública le pregunto por la valoración que le merece nuevamente la excesiva valoración que se le ha dado al euskera en esta oferta pública de empleo me dirá que está encantado me dirá que está encantado de

la euskaldunización en la administración pública en este caso en osakidetza y me dirá que avanzamos pero claro cómo no vamos a avanzar si los que entran en osakidetza saben euskera porque precisamente entran porque saben euskera imagino que me dirá esto pero obviamente pues luego le responderé pero usted sabe que al final

la exigencia del euskera en el nivel correspondiente y mucho más para aquellas que no saben euskera eskerrik asko garrido andrea

porque la valoración que le damos al euskera es exactamente la misma que la de la ope que sacó en osakidetza muy acertadamente

y que ustedes apoyaron entonces si entonces no le pareció mal la valoración

no debería hoy preguntarme esto pero le respondo el euskera no es un elemento discriminatorio

en osakidetza para dejar claro que de ningún modo puede considerarse el euskera un elemento discriminatorio

después de inscribirse y tomar parte en la fase de oposición en la fase de oposición

pasarán a la fase de concurso donde se valora con los méritos el euskera luego primero se demuestran los conocimientos y se aprueba la fase de oposición y posteriormente llegaremos a la fase del concurso

pasan todas las personas en idénticas condiciones para los aprobados es el momento de acreditar los méritos en base a lo establecido en las bases específicas y así

en la fase de méritos hasta un máximo de veinte puntos la formación la docencia y la investigación

y nueve puntos para quien acredita el pe ele uno non dago

gai berdina aurkezten dugu le voy a matizar si me permite pero nosotros no estábamos en el gobierno de patxi lópez

criticamos esa oferta pública de empleo y si no vaya a la hemeroteca y también puede repasar las iniciativas que presentamos en esta cámara nosotros criticamos esa

ir a un listado en la fase de oposición de preguntas fueron temarios abiertos y preguntas para desarrollar y el euskera sí pasaba a ser menos determinante que si son unas respuestas

y eso sí que lo aplaudimos pero desde luego no aplaudimos la exigencia o la excesiva exigencia que se

que se le dé al euskera de hecho y que este gobierno los gobiernos

obviamente como un gobierno nacionalista y que quiere imponer el euskera y que tiene la política lingüística de imposición que tiene al margen de la realidad sociolingüística y de la propia realidad

pues sigue por ese camino mire nosotros presentamos una iniciativa la misma que apoyamos con el partido socialista cuando sacó el vídeo criticando que usted lo recordará toda la política nacionalista del euskera en que nos quedamos solos y eso que era la misma iniciativa que apoyó el partido socialista la pasada legislatura pero mira si vamos a la fase de méritos

pe ele dos dieciocho puntos pe ele uno nueve puntos no me diga que el euskera no es absolutamente determinante usted viene aquí sacando pecho de las

qué oportunidades reales tienen esas personas de tener una plaza en osakidetza

usted sabe que además el euskera sirve para luego elegir destinos en los que precisamente no se exige euskera bueno señor consejero seguimos igual y el partido popular seguirá
poniendo esta realidad encima de la mesa eskerrik asko garrido andrea darpón jauna zurea da hitza

mire en euskadi tenemos dos lenguas oficiales la legislación reconoce unos derechos lingüísticos a todas las personas y este gobierno tiene un compromiso claro para avanzar en la normalización del uso del euskera y para garantizar a todas las personas

ha repetido en el primer turno de intervención y en el segundo turno de intervención que las personas que vienen de fuera no tienen ninguna oportunidad

ser doctor valdrá para la categoría de médico y de enfermería donde no está la mayoría de las plazas

claro que tiene valor ser doctor yo estoy convencido que las personas que vienen de fuera y que la recibiremos

no piensan que vienen a perder el tiempo y desde luego no tengo ninguna duda

para hacer deporte mire en el ámbito de la acreditación de los perfiles lingüísticos se aplica estrictamente lo establecido en el decreto sesenta y siete barra dos mil tres de normalización del uso del euskera en osakidetza decreto que cumple a su vez de manera rigurosa lo establecido en la ley diez barra ochenta y dos básica de normalización del uso del euskera y de la ley

leyes aprobadas por este parlamento lo cumplimos estrictamente señora garrido e insisto supongo que usted y yo no hemos venido hoy a discutir si las leyes emanadas de este parlamento

o no ni si son discriminatorias o no yo no tengo ninguna duda

parlamentarios consejeros consejera bien el pasado día viernes

una delegación de la comisión de cultura del parlamento visitó este singular y ejemplar museo del valle de ayala

la señora betolaza la señora molina el señor estarrona la señora agirre

comprobar una vez más pues el valor no de esa joya de

nuestras tradiciones y de esa cultura social muy cercana y ligada al ciudadano y

del valle de ayala no era la primera vez que la comisión de cultura del parlamento vasco se relacionaba con el museo etnográfico de

una delegación de la comisión de cultura con el señor

estuvimos con ellos en la antesala de lo que luego fue quienes dirigen y gestionan el museo la asociación artea una comparecencia que se celebró pocos días después prácticamente diez días después el veintinueve de febrero en dos mil doce en este parlamento no bueno y eso recientemente la pasada semana pudimos comprobar

cultural social del centro y de la asociación que lo gestiona y también pudimos comprobar una cosa clara que es quizás lo que en este momento nos traiga aquí

y la falta de apoyo institucional que sufre esta estructura infraestructura cultural artística y por eso se ve necesario

políticas o públicas es el más potente de los demás o de las administraciones que pueden tener algo que decir en la salvaguarda y la continuación de ese mueso además del cumplimiento de la ley de museos de euskadi de dos mil seis

que estamos viendo y que hemos podido comprobar que otras instituciones parecen no ser capaces de poder realizar

tampoco no ese es el motivo de esta interpelación el museo

desde luego lo calificaba antes de ejemplar y singular

muy auténtica una dimensión humana muy interesante y desde luego que a sus señorías que no hayan visitado

de esa precisamente de esa dimensión humana y auténtica que tiene

también singular porque interactúa

las gentes del valle de ayala y las que le visitan y con los estudiantes de diferentes

y yo creo que ese es el elemento fundamental eso es un centro cultural también ese centro que llamamos centros de arte o de cultura que interactúan con la ciudadanía pues muy palpable y muy gráfico de lo que es interactuar con la ciudadanía y

implicados como son los estudiantes con toda una serie de elementos desde los elementos que están ligados a la actividad agrícola o

las fraguas la elaboración del pan la alimentación tradicional aparte de otras muchas cuestiones

comprobar in situ y además

tiene otro reconocimiento social u otra importante

la colaboración ciudadana el impulso de jóvenes

impulsando una inicial colección que luego se convirtió en un museo

o sea que llevamos treinta y cuatro años con ese museo

con muchas personas voluntarias absolutamente altruistas en relación con su vinculación a ese museo ese museo creado en mil novecientos ochenta y cuatro

fue ampliado en dos mil cuatro mil setecientos metros cuadrados diecisiete salas una importante superficie

museística es decir un museo donde se concentran y se proclaman los modos de vida de los habitantes de la comarca

de ese núcleo urbano de los negocios el baserri o todo lo que funcionaba alrededor de esa economía

en tiempos pasados y además todo eso ha sido fruto de esa colaboración popular o sea que estamos señor consejero ante un centro de cultura popular y de arte popular y de vida

del valle de ayala y de álava y del país vasco porque son muy similares a las que compartíamos todos y todas nosotros y nuestros antepasados es decir

los concursos como el de pintura las exposiciones temporales

donde se celebran también determinadas manifestaciones que tienen que ver con la naturaleza

del año o sea que en ese sentido un museo y un centro de arte popular

y auténtico es decir entonces y además tiene un valor no se centra en lo que es el esfuerzo habitual y normal de que todos estos centros de cultura y de arte suelen estar generalmente en los núcleos grandes en las ciudades pues habitualmente bueno hay más gente

cultural también tiene que ser dirigido a nuestros pueblos a nuestras comarcas en este caso a nuestras cuadrillas y esa es la

conocemos también de que hubo una pregunta parlamentaria ya se respondió en su momento algunas de las cuestiones que se planteaban

con situaciones económicas o con aportaciones y subvenciones del gobierno vasco bueno ahí está la pregunta parlamentaria y la respuesta pero en cualquier caso

un tiempo aproximadamente un año estamos en condiciones después de esta visita además de trabajar para ver qué se puede hacer qué se puede hacer en relación con ese museo es un museo que está atravesando unas pequeñas dificultades vuelvo

pero que tiene un valor y una carga cultural muy importante

que en relación con cuáles son los propósitos de su departamento en relación con el mantenimiento y la sostenibilidad del museo etnográfico de artziniega sí que entendemos que será una respuesta que valoraremos convenientemente

de buscar un acuerdo parlamentario a través de una moción que esperemos

que pueda dar cauce a un futuro despejado de

esta infraestructura cultural muchas gracias eskerrik asko barrio jauna erantzuteko zupiria jauna zurea da hitza

legebiltzarkideok sailburuok barrio jauna egun on ante todo y se lo digo de verdad me parece interesante que traiga usted este tema a esta cámara porque al margen de lo que hoy hablemos y discutamos

creo que estamos ante una buena oportunidad para repasar en el ámbito de la cultura

y de repasar también la responsabilidad que cada institución tiene o debe tener en las políticas públicas que impulsamos desde cada una de ellas porque en el fondo este es el tema que subyace en la interpelación que me plantea usted

haciendo una referencia al modelo de gobernanza es un modelo complejo y singular que nos hemos dado en la comunidad autónoma vasca y precisamente en la materia que hoy nos trae aquí que es la competencia relativa a la gestión de la cultura y en ella encaja la política museística

entre nuestros tres niveles institucionales el gobierno vasco las diputaciones forales y los gobiernos locales y intervienen en ella y se entrecruzan y combinan dos modelos de propiedad uno gestión y otro privado

el hecho de que la competencia vasca en materia de cultura sea una competencia compartida en cualquier caso en la que existe una concurrencia entre diferentes instituciones

es un modelo en el que cada institución debe responsabilizarse y asumir las consecuencias o las exigencias de su ámbito y las políticas públicas deben ser

y haciendo referencia a las políticas públicas en materia de museos es bueno recordar que la comunidad autónoma vasca

la competencia exclusiva en materia de museos pero a pesar de ello el gobierno no tiene ningún museo ni ha fundado ni ha creado

y hasta el momento no se ha implicado de manera directa en la gestión de ningún museo de titularidad privada o social son por tanto

y colecciones de titularidad pública de nuestra comunidad y diputaciones y ayuntamientos asumen la responsabilidad de dar cobertura y apoyo

en cualquier caso esta comunidad autónoma tiene la ambición de desarrollar e impulsar un sistema de museos competitivo competente y avanzado y ello impone a muchas de estas instalaciones museísticas y colecciones sean públicas o privadas

o por sí mismas no podrían asegurar y en este complejo sistema de gobernanza el gobierno vasco tiene asumida la responsabilidad de impulsar programas que permitan a los titulares de los museos

o privados desarrollar proyectos dirigidos a reforzar la importancia y el valor de las colecciones y a fomentar programas educativos o divulgativos que faciliten la participación de la ciudadanía en su disfrute y conocimiento

asumido y adjudicado el gobierno vasco y en ese ámbito se desarrollan sus políticas este modelo de gobernanza tiene muy pocas excepciones

por sus características singulares es el caso guggenheim bilbao museoa el museo de bellas artes de bilbao el museo artium de vitoria

el gobierno a través del departamento de cultura interviene de manera diferente en cada uno de ellos aunque

en las fundaciones que se responsabilizan de su gestión y contribuye a su financiación a estos hay que añadir el museo san telmo

y la fundación catedral santa maría el gobierno

de estas entidades pero contribuye a su funcionamiento con una financiación especial como ve son muy pocas excepciones son unos casos muy concretos y creo que nadie pondrá en duda la relevancia de los mismos por su capacidad de arrastre sobre otras actividades de todo tipo y por el número

este esquema tiene dos excepciones en el presupuesto del año dos mil dieciocho y ambas excepciones responden a dos enmiendas presentadas por su grupo parlamentario y son el museo etnográfico de artziniega y el museo marítimo de la ría de bilbao

y en mi opinión en nada ayudan a dar coherencia al sistema nacional de museos que tenemos organizado pero en fin como grupo de oposición que acepto la negociación presupuestaria están ustedes en su derecho y consiguieron que se incorporaran a nuestro presupuesto el resto de los museos vascos

reciben de las diputaciones y los ayuntamientos o de las diferentes entidades privadas y sociales que los sustentan los recursos que necesitan para asegurar sus gastos corrientes

programas de ayudas destinados a ellos

gestionar las colecciones y mejorar el acceso al conocimiento de las mismas renovar la exposición permanente realizar exposiciones temporales impulsar la función educativa lúdica y cultural en su ámbito de actuación generar conocimiento relacionado con su temática y ámbito de actuación y mejorar la gestión

dos mil dieciocho será aprobada por el consejo de gobierno el próximo martes y crecerá

y cada uno de los museos podrá solicitar ayudas para dos proyectos

a la convocatoria del año dos mil diecisiete se presentaron treinta y ocho proyectos organizados o dirigidos por veintitrés museos

volviendo al museo etnográfico de artziniega en los años comprendidos entre dos mil tres y el año dos mil trece

públicas del gobierno en ocho de las once convocatorias realizadas en el periodo comprendido entre el dos mil catorce y el dos mil dieciocho como consecuencia de las diferentes negociaciones presupuestarias

y ha recibido subvenciones nominativas en el presupuesto por valor de treinta mil euros por año yo también he visitado el museo de artziniega

con los representantes de la asociación artea y también con el alcalde del municipio cuyo ayuntamiento es el titular de la instalación en la que se alberga el museo estoy de acuerdo con usted en que es un museo muy interesante es interesante porque en primer lugar

y a las aportaciones desinteresadas de muchos de los habitantes del municipio y de la zona es también importante y destacada

que contiene y me parece también muy original la forma de presentarlos situándolos en unos contextos determinados que hacen más

y además en muchos casos son herramientas que aun hoy funcionan y las ponen en marcha

para que los ciudadanos que se acerquen tengan un conocimiento de cómo se desarrollaba la vida en esa zona ahora admitido el interés

en ningún caso se me ocurriría poner en duda la interés de otras instituciones

no pondría en duda el interés del museo etnográfico de larraul no pondría en duda el interés del museo de la sal de leintz gatzaga ni el del foto museum de zarautz el museo de la ría de bilbao

ninguno de ellos y los he elegido con intención pero una cosa es mi opinión y otra

el interés de cada uno de ellos y el modelo de gobernanza que debió regir en la organización

ubicado en un edificio de titularidad municipal y el propietario de la colección y de su filosofía es una asociación social o privada como ha dicho usted artea lo lógico sería que el ayuntamiento de artziniega y la asociación etnográfica artea alcanzaran un acuerdo

y obtuvieran además el apoyo económico de la diputación y que finalmente se presentaran a las convocatorias públicas del gobierno para el desarrollo de sus programas

y de mejora de su colección creo que el museo tiene capacidad técnica suficiente para presentarse a esos concursos y obtener las ayudas solicitadas eskerrik asko

gracias presidenta y agradecer al señor zupiria señor

y constatar que compartimos el interés desde luego que sí compartimos el interés por el museo de artziniega y también por otros museos algunos de los cuales

también conozco y también le agradezco la reflexión sobre y su intervención sobre el modelo de gobernanza en relación con los museos

de apoyar esta iniciativa concreta en relación con un museo nos fundamentamos en lo que la propia ley

infraestructuras museísticas está muy claro el artículo uno de la ley

como nosotros estamos aquí y leemos la ley que es de este parlamento le preguntamos a usted que es el consejero y además que

de la cultura pero el papel del gobierno vasco tiene un papel por su potencia o por su capacidad por

económica y también en la promoción del patrimonio histórico artístico de liderazgo en relación con estas cuestiones

y además efectivamente lo que no hay en la cultura son duplicidades y además no hay duplicidades porque también el propio artículo uno de la ley de museos en su punto tres habla del principio de colaboración y ese es el elemento fundamental que nosotros entendemos

u otros museos el de salduondo los que usted ha ido detallando pues puedan tener una seguridad en el tiempo la colaboración institucional y la público privada

y asociaciones altruistas y en ese sentido también hay que garantizar ahí ese modelo de gobernanza efectivamente el gobierno no ha fundado ni creado

o un liderazgo en cuanto a ese principio de colaboración al que se menciona

no estamos hablando de excepciones yo creo que estamos pidiendo una implicación realista en relación con lo que usted ha dicho también de la gobernanza pero también en relación

con lo que la propia ley de museos dice la ley de museos dice

como elemento fundamental que son los objetivos de la defensa la promoción del patrimonio museístico con garantía de la ciudadanía de acceso a la cultura y la educación elementos que entroncan con las necesidades que tiene

del patrimonio museístico como testigo de nuestra historia nada que entronque mejor con este tipo de iniciativas como la que yo le he presentado y con muchas otras el museo de

social historia cultural más cercana ligada a las costumbres ligada a la tierra

que nosotros queremos poner en valor

en valor porque también el gobierno vasco ha estado implicado ha estado implicado con el resto de instituciones ha estado implicado en su desarrollo tenemos que recordar

al principio de la segunda etapa de la segunda andadura del museo como el lehendakari ibarretxe estuvo allá la consejera azkarate también en aquella

al frente no de lo que era la implicación también pues supongo que el señor ibarretxe como

ibarretxe el veinticuatro de febrero también volvió a allá o sea que la implicación en relación

que los dos hemos compartido en relación con ese museo está ahí qué

negociamos una moción o cómo lo planificamos o lo planteamos con la ayuda de los grupos parlamentarios pero creemos que hay que poner

del gobierno vasco es decir estamos hablando de museos que tienen que

de instituciones muy pequeñas o relativamente pequeñas pues un

nosotros intentaremos llegar a un acuerdo pues para que esa alerta que dio la asociación en dos mil dieciséis desde luego no termine

se despierte ahora en sus filas porque si este mismo interés lo hubiera manifestado el partido popular

y no hubiera reducido las ayudas al museo al mínimo creo que bajaron de veinte mil euros el año dos mil once a cinco mil

el catorce y el quince seguramente la situación de ahogo y asfixia que tiene ese museo no se habría producido y lo mismo podría decir

y dos mil once en los que ustedes algo tuvieron que ver con la gobernabilidad del gobierno y no hubo tampoco fondos del ejecutivo vasco para este museo pero bueno me parece bien que miremos hacia adelante y

y de que usted cree en la colaboración entre los diferentes niveles institucionales y creo que usted y yo coincidimos en que no deberíamos repetir las operaciones o las acciones que hagamos unos y otros y que estas deberían ser complementarias usted me habla de la ley yo creo que la ley en este sentido es muy clara en ese artículo tres que usted me ha leído

que la administración colaborará con el resto de instituciones y administraciones en orden al fomento y mejora

no dice que tenga que asumir los gastos corrientes de funcionamiento de un museo

es donde se producen las convocatorias anuales de ayudas a los museos que antes le he comentado y que establecen unas acciones muy concretas que

como son la documentación a la colección la documentación de la colección la actualización de la exposición permanente las exposiciones temporales actividades didácticas y lúdico culturales trabajos de investigación edición y traducción de contenidos científicos ahí es donde la ley establece un ámbito para desarrollas las políticas públicas del gobierno y creo que es ahí donde debemos movernos

que yo no le puedo negar por supuesto de plantear la reflexión que le parezca oportuna sobre esta cuestión

pero le invitaría a no crear precedentes discriminatorios creo que el intentar ayudar a un museo como

y olvidar a todos los demás no hace más que crear situaciones de diferencia que en nada ayudan

las instituciones museísticas ni a poder coordinar este ámbito con cierto cuidado y me parece muy bien que plantee una moción para la financiación

y yo intentaré que los grupos que apoyan al gobierno pues asuman las orientaciones que yo le he explicado aquí

si lo hace solo le voy a pedir que no se olvide

de rialia museo de la industria del museo ibarraundi

de zerain paisaje cultural del museo cementos rezola de los museos diocesanos de arte sacro de bilbao y de vitoria

del museo historia de la medicina de luberri de soinuene del museo de la minería

del museo de la industria armera etcétera etcétera hasta cuarenta y cinco

y no creemos situaciones discriminatorias que creo que en nada favorecen a nadie más allá de un interés coyuntural y muy concreto eskerrik asko

hemos preguntado muchísimas veces sobre la justicia gratuita y sobre el decreto de justicia gratuita por escrito también porque es una cuestión fundamental porque hay que cambiar

porque los formularios son imposibles de llevar a cabo porque hay quejas porque el decreto está sin hacer nos dijo usted por escrito en enero del dos mil dieciocho

del dos mil dieciocho el decreto sigue sin hacer no sabemos a qué se debe el retraso ayer le oía a usted decir que va a estar en julio en vigor bueno no sé

los decanos de los colegios han hablado con usted y nos han comentado que parece que ya está pero es que ese decreto ni tan siquiera lo han redactado ustedes porque lo han hecho los colegios de abogados

y no han cumplido tampoco lo que dicen y todavía estamos esperando a ver qué pasa con una cuestión primordial sobre los juzgados de violencia de género se plantearon cuestiones de las que usted nos ha respondido en el informe que nos traen sobre cumplimiento de esos planes pues en relación a esta cuestión

ustedes mirando qué es lo que van a hacer y que siguen analizando y viendo qué es lo que van a hacer

en un momento como poner una máquina de agua

es decir las cosas normales y sencillas todavía están sin hacer ya no le hablo de un turno mayor

ya no le hablo de otra serie de cuestiones porque las más fáciles tampoco están hechas también nos habló y le hemos preguntado sobre cuestiones relativas al euskera

que a día de hoy es imposible imposible

pero nos dijo entonces que era primordial y nos habla del dinero que va a destinar para esa cuestión le hemos preguntado también sobre cómo van a plantearse los puntos de encuentro y usted también nos ha dicho

señora goirizelaia voy a ser rotunda en la respuesta a su interpelación

corresponden al departamento de trabajo y justicia son absolutas además creo que lo estamos demostrando en el día a día y le voy a decir más no se trata de intenciones sino de hechos y espero que a la luz de los argumentos que le voy a dar

respecto al funcionamiento de los juzgados de violencia sobre la mujer tengo que decirle como más adelante le repetiré que es una de las cuestiones que más dedicación para el departamento en cuanto al cumplimiento de sus competencias que como usted sabe son de medios materiales y personales a la administración de justicia somos perfectamente conscientes de los problemas que se suscitan en este ámbito uno de las que más resultan es la adecuación de los edificios

de las víctimas y la conveniente separación entre víctimas y victimarios así como a la atención integral a las víctimas al respecto puede decirle que se han revisado todos y cada uno de los palacios de justicia

en orden a proceder a la adopción de medidas para garantizar dentro de lo posible esa separación de las partes y la protección de las víctimas y trabajadores

que fundamentalmente tienen que ver con las posibles utilizaciones de las salas multiusos

reestructuración de salas de espera y de testigos y transformación de algunas posibles dependencias en zonas restringidas de las propias unidades de apoyo directo y otras he de decirle asimismo que estamos requiriendo los apoyos de los operadores jurídicos

jueza de violencia letradas directores o en su caso coordinadoras responsables de seguridad y personal para

los programas funcionales requeridos como consecuencia de ese análisis y también de la colaboración como no puede ser de otra manera de los operadores jurídicos se han realizado las obras del nuevo palacio

en el palacio de justicia de vitoria del juzgado de violencia que están pendientes de la inauguración no tengo tiempo

esta labor queremos extenderla al resto de los edificios judiciales y se ha constituido un grupo de trabajo de edificios judiciales formado por magistrados

entre todos están valorando elaborar un plan general sobre adecuación de edificios de los espacios de todos los edificios judiciales

son las dependencias destinadas a la acogida de las personas que acudan en calidad de perjudicadas víctimas con especial atención a las de violencia de género

con el afán de atender no solamente las necesidades físicas sino también las personales el servicio de atención a la víctima está ofreciendo un servicio de acompañamiento terapéutico psicosocial de apoyo a la persona víctima en su contacto con las instancias judiciales que se realiza en el periodo anterior al proceso en la fase

pretendemos con ello cumplir con el compromiso de que la víctima se encuentre acompañada en todo momento

tipos de acompañamiento insisto señora goirizelaia el objetivo es la instauración de un nuevo servicio de acompañamiento integral

en relación a los puntos de encuentro familiar por derivación judicial tengo que puntualizarle también que desde el inicio de la actual legislatura del departamento de trabajo y justicia constatamos y dejamos clara

familiar y dotar de todos los medios humanos y técnicos y materiales necesarios para su funcionamiento como

contactos con representantes municipales de la mancomunidad de durangaldea

su colaboración hoy todos ellos son ya una realidad en el mes de enero de dos mil dieciocho se inauguraron los nuevos locales de bilbao que han mejorado

mancomunidad durangaldea lea artibai y por otro lado están ya en distintas fases administrativas el de tolosa y el que dará servicio a la mancomunidad

con el ánimo de mejorar también el funcionamiento de este servicio en el año dos mil diecisiete

la circular uno barra dos mil diecisiete de la dirección de justicia las normas de funcionamiento de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial en sus apartados de horarios personas usuarias normas de convivencia y cuidados de los menores modificaciones de convenios o cumplimiento en caso de existencia de órdenes de protección alejamiento y comunicaciones

para concluir este apartado voy a adelantarles que en breve que estará concluido el informe evaluativo del servicio correspondiente al año dos mil diecisiete y espero que los datos

del valor de los puntos de encuentro familiar por derivación judicial paso ahora a relatar la situación de otro de los temas que nos ha ocupado desde el primer momento tanto a mí como a las personas responsable directas del área de justicia

expresarle una cuestión de principios y es que el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita es

público esencial que garantizamos con más de quince millónes de euros para que las personas en situación de vulnerabilidad accedan gratuitamente a la administración de justicia

y es el desarrollo de un texto que tiene su inicio en el año dos mil catorce a raíz de una propuesta del consejo vasco de la abogacía durante los años dos mil quince dos mil dieciséis

que convendrá conmigo constituye la base de un sistema que permite el acceso a la justicia a toda la ciudadanía con independencia de que pueda pagarla o no este decreto incorpora

operados en las recientes reformas estatales tanto en materia de enjuiciamiento civil como en el régimen de tasas en el ámbito de la administración de justicia y corrige las disfuncionalidades practicas detectadas

tanto para la ciudadanía como para los colegios de abogados y procuradores y para las comisiones de asistencia jurídica gratuita a quienes corresponde la gestión administrativa de los procedimientos el decreto persigue la máxima agilidad y eficacia en la gestión del sistema de justicia gratuita

se inició la tramitación que tiene los siguientes pasos fundamentales septiembre de dos mil dieciséis firma por parte del consejero de administración pública y justicia de la orden

requiriendo los diferentes informes preceptivos como el impacto de género o la memoria económica a finales de junio de dos mil diecisiete firmé la orden de aprobación previa y a partir de ese momento

al consejo general del poder judicial consejo vasco de la abogacía el consejo de procuradores del país vasco y a los colegios

han sido revisados y se han solicitado los informes preceptivos a la

y posteriormente se solicitó el informe a la oficina de control económico que está a punto de recibirse con lo que quedaría el de la comisión jurídica asesora señoría

dilatado pero si queremos dotar de garantías jurídicas a los procedimientos que iniciamos debemos cumplir rigurosamente con lo establecido en la leyes de todas formas puedo anunciarle

esté publicado en el boletín oficial de la comunidad autónoma con respecto a las cuestiones que ha planteado trasferencias penitenciarias euskera

y en nuestra atención diaria nosotros no hacemos dejación de nuestras funciones sino que precisamente las atendemos

requieren de decisiones que no son unilaterales sino que abarcan a un escenario mucho más amplio

coordinar y desde luego llegar a un consenso con todos los que tienen que tomar decisiones en cuestiones

señora consejera tenga usted claro que si yo pensase que usted hiciera dejación de sus funciones

estaría pidiendo su dimisión por eso le estoy preguntando porque creo que algo hace y porque

pues le hago preguntas y le propongo cosas y espero que usted las tome en consideración y las lleve adelante usted mire

ha repetido la palabra posible posible posible estamos haciendo lo posible vamos a hacer lo posible queremos hacer lo posible seguimos haciendo lo posible

quiero decir es la plasmación de lo que yo le estoy diciendo siguen ustedes haciendo reuniones y haciendo cosas y hablando con la gente pero estamos haciendo lo posible pero

se hace realidad y se hace concreto seguimos recibiendo informes seguimos hablando con unos con otros pero las cosas siguen ahí como estaban me dice usted no le voy a hablar de las obras no no si yo no le digo que me hable de las obras yo lo que le pregunto es lo que aquí se decidió que se iba a hacer

cómo está se habló de la creación de nuevos juzgados se habló de ampliar el turno de oficio se habló de adecuar desde el primer momento cosas

y todo eso no son obras son otras cosas y usted me habla de las obras de gasteiz pues bienvenidas las obras que seguramente estarán mejor que como estaban espero porque como sean como las upad

pero si son de otra manera pues igual hasta tenemos que decirle que está bien porque lo que usted haga bien se lo vamos a decir lo que pasa es que aquí estamos para decirle lo que usted no hace mire

estamos hablando de otras cosas muy concretas y muy determinadas a las que ustedes no dan

me habla de los puntos de encuentro y me dice en el dos mil diecisiete empezamos a hablar con lea artibai e hicimos contactos abril del dos mil dieciocho

seguimos haciendo contactos para solucionar esa cuestión importante muy importante puesta de manifiesto aprobada aquí en otro sitio

bueno pues vamos a ver si eso de los tiempos también lo podemos corregir me dice

que había que cambiar las normas de funcionamiento y que le parece a usted que eso es una labor muy importante efectivamente estoy de acuerdo

con la asistencia jurídica gratuita son cuestiones muy importantes pero mire usted lo que me ha dicho que empezaron a hablar de esta cuestión en el año dos mil catorce y estamos a abril del dos mil dieciocho yo he visto juicios más rápidos que estos

años para hacer informes y hacer cosas de algo que se detectó que estaba mal y que necesitaba modificación y desde que usted me ha dicho que se va a hacer enero del dos mil dieciocho fue lo último que me dijo

y entonces me dice usted que todo esto tiene que ver con la garantía jurídica

es la no dilación las dilaciones van en contra de las garantías jurídicas y aquí lo que hay es una dilación total y absoluta de

pero claro sí tardamos cuatro años en hacer esto pues fíjese estamos todavía como estamos y seguimos esperando ese decreto porque usted me dice que va a salir en julio pero ya veremos ya veremos porque igual en septiembre

mire yo de lo que usted me

a lo que hacemos prácticamente la mayoría de las personas en el mes de enero cada año hacemos una lista y décimos voy a dejar de fumar

voy a hacer esto voy a hacer lo otro y décimos qué buenas intenciones tengo voy a hacer todas estas cosas y pasa un año y al año siguiente volvemos y volvemos a hacer la misma lista porque resulta que no hemos hecho nada y esto es lo que pasa aquí señora consejera hacemos una lista de las cosas que tenemos que hacer

a lo que he comentado en mi anterior intervención nuestra en materia de administración de justicia es la administración de la administración de justicia que es la dotación de medios personales y materiales a los órganos

que el entramado complejo de la transferencia con respecto a cuántos poderes de decisión hay

es importante tenerlo en cuenta de cara a cualquier actuación que intentamos realizar pues bueno eso supone

tenga que informar le diré como dato que las obras en el palacio de justicia para separar el palacio de justicia de vitoria para separar a las víctimas y a los

diez proyectos tengo

reconocerle también que me gustaría que alguna de las o casi todas pudieran implementarse con mucha más celeridad pero eso no limita nuestra voluntad desde luego de mejora continua

propuestas que se hagan para mejorar nuestros servicios voy a procurar en el tiempo que dispongo seguir dándole más datos de lo que estamos haciendo y de lo que estamos poniendo en práctica

y aparte de los programas y tutorías de formación específica a los funcionarios en las cuales se viene realizando habitualmente

con el objeto de solicitar asesoramiento sobre los posibles contenidos y desarrollo de una actividad formativa

al objeto de darles una visión integral en materia de violencia de género comprender el ciclo de la violencia sus mecanismos sensibilización

asimismo se ha pedido asesoramiento sobre personas y empresas para llevarlo a cabo en la

se nos pedía también reforzar de medios personales los juzgados que atendían la violencia de género pues bien entre octubre de dos mil diecisiete

los diferentes cuerpos de gestión tramitación y auxilio los llamados refuerzos indicarle que este aumento de plantilla ha constituido la respuesta a la solicitud

en estos momentos son ciento tres personas las que atienden los juzgados de violencia de género también y con la intención de operar en la mejora de la asistencia a las mujeres

de asistencia jurídica a víctimas de violencia doméstica de género y agresiones sexuales

es un compromiso compartido por último

remarcar que las obras del palacio de justicia van a ser un ejemplo que pretendemos ampliar en la medida que las circunstancias lo permitan al resto de palacios

de nuestra comunidad para finalizar

del departamento de trabajo y justicia mi completa disposición a colaborar y a tener en cuenta sus iniciativas como ya he dicho para mejorar
el servicio de justicia a la ciudadanía mila esker eskerrik asko

sí en primer lugar quisiera aprovechar la tribuna para expresar la

capaces de cometer violaciones porque todas y todos sabemos que la sentencia que ayer conocimos dictada por jueces

sabemos todas y todos que es una violación estoy seguro que la consejera san josé también comparte esta opinión señora san josé desde que se firmó el acuerdo de gobierno entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista para esta legislatura hemos venido escuchándole a ustedes y en especial a usted como consejera de trabajo al importancia que supuesta tiene para el gobierno el diálogo social y sin embargo

el gobierno quienes han acabado de dinamitar ese diálogo social diálogo social que por otra parte tampoco habían conseguido que fuera precisamente el mejor ejemplo de buen entendimiento entre las partes a excepción del

y la patronal como nuevamente se ha evidenciado estos días una vez más nos encontramos con un gobierno que rellena los papeles con buenas intenciones en cuanto a las relaciones laborales pero que luego en su práctica cotidiana demuestra que hace todo lo contrario como se ha demostrado estos días entre los principios de inspiradores del acuerdo de gobierno que le llevó a usted a dirigir el departamento

y la consolidación para ello de un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales este gobierno ha actuado en sucesivas ocasiones de manera abierta contra ese principio que plasmaron en su acuerdo

despreciando diferentes posiciones de los agentes sociales hasta el punto de reprocharles que tengan opinión sobre diferentes cuestiones sobre las que ustedes consideran que no deberían opinar contra esos principios también ha venido actuando este gobierno cada vez que hace recaer sobre la espalda de los sindicatos toda la responsabilidad sobre la falta de diálogo social o sobre la falta de acuerdos cuando no los hay veintiocho de octubre de dos mil diecisiete los sindicatos comisiones obreras ugt y lab

que excusaron asistencia por no poder venir ese día comparecieron

y en esa ocasión criticaron la gestión del gobierno y denunciaron que el gobierno vasco no les haya dado voz

a tal fin se comprometieron con un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales integrado por el gobierno vasco las organizaciones sindicales y las empresariales

entre los principales sindicatos algunos decidieron participar en la mesa de diálogo social

un espacio donde dirimir las diferencias con la patronal y donde abordar las cuestiones relacionadas con las políticas públicas socio laborales también con el gobierno

entendieron que esa mesa no cumplía los criterios necesarios para ser una herramienta eficaz y no estaban por ello en la misma el departamento de trabajo y el gobierno del que forma parte usted en ningún momento se han planteado queé hacer para conseguir una eficaz mesa de diálogo social donde todas las partes consideraran que era oportuno estar y aun así se la han cargado se han cargado la mesa de diálogo social existente al actuar nuevamente de parte han negociado unilateralmente con la patronal ignorando a todos los sindicatos del país a los que participaban en la mesa y a los que no participaban han negociado con la patronal marginando a las centrales sindicales y han llegado a un acuerdo solo con confebask

teniendo en cuenta única y exclusivamente las necesidades formativas planteadas por la patronal los sindicatos

y la patronal por los siguientes motivos parte de un diagnóstico de parte un diagnóstico no consensuado con nadie nada más que con la patronal y que responde únicamente a las necesidades precisamente

el gobierno se limita a aceptar las demandas de los empresarios pone en bandeja a las empresas poder disponer de trabajadores gratis de forma casi permanente

se hizo público ese acuerdo entre el gobierno vasco y la patronal denominado acuerdo marco de colaboración por el empleo y la cualificación en euskadi dos mil dieciocho dos mil veinte en su elaboración y firma ha participado el gobierno al más alto nivel el lehendakari iñigo urkullu acompañado de las consejeras de empleo

de desarrollo económico y la consejera de educación justamente las consejeras que estaban con usted cuando se firmó el acuerdo de la mesa de diálogo social más allá de que hoy el lehendakari reconozca

nosotros no compartimos lo que ha dicho esta mañana esto no es un acuerdo abierto como ha dicho el lehendakari en ninguna democracia del mundo hay un acuerdo entre gobierno y patronal para luego decirle a los sindicatos simplemente que se sumen la posición del acuerdo ya la ha marcado la patronal y por tanto

y ustedes lo fomentan lo toleran y lo permiten ustedes consensuan de forma bilateral un acuerdo que se extiende hasta el año dos mil veinte con la patronal

previamente eso no es serio y es una vergüenza democrática no se les puede decir a los sindicatos que se sumen a algo que ya han firmado ustedes con la patronal

qué explica si no la reacción de los sindicatos estos días señora san josé se lo pregunto de otra forma esta deslealtad

en la firma del acuerdo usted no estaba como consejera de trabajo usted como consejera socialista está de acuerdo con los contenidos

y sobre todo está de acuerdo con las formas en que se ha llevado a cabo comparte usted que se firme ese acuerdo a espalda de las centrales sindicales y ninguneando no solo a las mismas sino también

que dice usted impulsar y defender constantemente para la consecución de dicho acuerdo el gobierno no ha contado con ninguno de los principales sindicatos y se ha ninguneado como digo al órgano permanente de diálogo social a la vista de lo sucedido una de las principales apuestas de su departamento en el ámbito de las relaciones laborales el debate y la toma de decisiones compartidas de políticas públicas con los agentes sociales está resultando un fracaso estrepitoso y entiendo que usted

nosotros hoy queremos saber si tiene usted intención de reconocer la responsabilidad de su departamento y del gobierno vasco del que forma parte en la ruptura del órgano permanente de diálogo social

dando carta blanca al acuerdo gobierno patronal que la ha dinamitado o de lo contrario ha sido usted traicionada por sus propios compañeros y compañeras de gobierno en cuyo caso yo me pregunto cómo puede usted aguantar

en un gobierno que la traiciona si es así y si no es así sería usted la máxima responsable de esta cuestión eskerrik asko

y sobre las responsabilidades de la misma he de reconocer señoría que mi respuesta es bien sencilla

además creo que es una posición que puede hacerse extensiva al conjunto de este gobierno vasco en primer lugar permítame contestarle de manera inmediata

es una decisión de ambos sindicatos que como usted sabe por lo que he dicho públicamente no comparto son decisiones que no comparto y por ello desde el primer momento les he solicitado que vuelvan a la mesa de diálogo social

todo lo que esté en mi mano para que así ocurra el departamento de trabajo y justicia efectivamente es el competente en materia de diálogo social y puedo asegurarle que es una labor que desempeñamos

de la necesidad de su desarrollo y consolidación entendemos la concertación social como elemento imprescindible para el avance del conjunto de la sociedad

una idea la de establecer acuerdos entre los agentes sociales y los gobiernos

la organización internacional del trabajo la oit que es la única agencia dependiente de la organización de las naciones unidas cuyos participantes representan a gobiernos trabajadores y empleadores creemos más que nunca que no hay respuestas que puedan afrontar los grandes retos que tiene euskadi que tenemos los vascos y las vascas sin el compromiso de los agentes sociales y del gobierno sin acuerdos que hagan posible una verdadera transformación económica y social

hechos y acuerdos que lo avalan referencias y compromisos sobre el diálogo social están plasmados en los documentos más importantes que sustentan el actual gobierno vasco el segundo de los seis principios inspiradores del acuerdo político entre mi partido el partido socialista de euskadi euskadiko ezkerra y el partido nacionalista vasco dice textualmente

acompañada impulsada mediante el diálogo social consolidando un marco permanente de negociación entre los agentes económicos y sociales y reforzando el sistema vasco de relaciones laborales

y en el que decíamos impulsar el diálogo social y la participación de los trabajadores en las empresas reforzando los programas de apoyo económico incentivos fiscales

el diálogo social se constituye como el mejor instrumento para la concertación de las políticas públicas en materia socio laboral entre el gobierno y los agentes sociales a tal fin se creará un órgano permanente para el desarrollo de la participación institucional de los agentes sociales integrado por representantes del gobierno vasco y las organizaciones sindicales y empresariales más representativas que manifiesten su voluntad de participar institucionalmente en el mismo como no podía ser de otra manera estas ideas y compromisos se trasladaron al documento euskadi dos mil veinte programa de gobierno para la once legislatura

con un compromiso sexto con seis iniciativas que se refieren al sistema vasco de relaciones laborales a la promoción del diálogo social y al impulso de la negociación colectiva pero voy a decirle más

hemos tenido para ratificar nuestra apuesta por el diálogo social así lo hemos hecho y como muestra voy a referirme al programa marco por el empleo y la reactivación económica

el ámbito operativo ocho para la mejora de la calidad del empleo sus dos primeras líneas de actuación prioritaria se establecen la participación institucional en el diálogo social

hemos asumido con absoluta lealtad y convencimiento los acuerdos alcanzados en la pasada legislatura los acuerdos de veintidós de julio de dos mil dieciséis y que hemos querido ratificar en la reunión que yo misma convoqué el dieciocho de julio de dos mil diecisiete a partir de ahí nos hemos

en la búsqueda de acuerdos hemos constituido grupos de trabajo que se han reunido en el consejo de relaciones laborales con la garantía que ofrece su participación en estos grupos de trabajo

requieren de tiempo y desde luego mucha negociación para muchos seguramente con demasiada lentitud pero siempre se han tratado con la voluntad de acordar todo esto da lugar

menosprecien la mesa pero a ellos hay que recordarles que no hubiera existido el acuerdo interprofesional del diecisiete de enero sin el antecedente de los acuerdos de la mesa de diálogo social del dos mil dieciséis por cierto espero que no haya quedado margen de duda sobre la defensa firme y contundente que hice de ese acuerdo el pasado pleno de control

me siento orgullosa de haber contribuido como creo que así ha sido a que la patronal demandante haya retirado la impugnación sobre el acuerdo interprofesional

agriamente atacados acuerdos repito del año dos mil dieciséis apartado protección del ámbito vasco de negociación dice lo siguiente para proteger

a lo negociado en los distintos territorios de la comunidad autónoma de euskadi otorgar prioridad y hacerlo con la mayor amplitud posible a través de un acuerdo intersectorial de estructura

en otro ámbito superior aquellos contenidos que libremente las distintas mesas de negociación sectorial sean capaces de acordar

apostamos por un acuerdo interprofesional de estructura que permita una aplicación real y efectiva de los convenios territoriales de eficacia general que se suscriban en la comunidad autónoma de euskadi con esta exposición trato de convencerle de la importancia que tiene de por qué es básico

es la demostración palmaria de que los acuerdos que se consiguen en ella pueden trasladarse posteriormente a otros ámbitos

de nuestra línea de actuación creemos en los acuerdos tripartitos y vamos a seguir impulsándolos venciendo todas las dificultades que se puedan dar y con respecto a la cuestión que me ha planteado la opinión que yo tengo respecto a la reciente sentencia el juicio de

que respeto las actuaciones de la justicia

y esa ha sido es y será una norma de conducta desde luego y

de mi responsabilidad institucional pero dicho esto desde esta afirmación y comportamiento y también desde mi responsabilidad política para intervenir en ella política y legislativamente también tengo la determinación

y situaciones donde considero que la protección de los derechos fundamentales de las personas tienen fallos carencias y donde los sucesos no tienen el tratamiento que una sociedad moderna merece de la justicia un código penal cuya elaboración y en su caso modificación depende de la política en este caso nuestro no me cabe duda que está hecho con tal consideración sobre el género humano que en casos puntuales

desbordado por las barbaridades y atrocidades que algunas personas pueden llegar a cometer cuando así sucede la política tiene que cumplir con su función técnicamente no voy a opinar sobre la misma pero

y sí puedo considerar y considero que nuestro estado de derecho bien sea en instancias de garantías superiores o en la iniciativa legislativa de gobierno cortes generales sí que está emplazada a revisarlo y a dar cobertura y garantías ante delitos

se aprecie falta de concreción o tratamiento inadecuado a mi juicio político desde luego

solo pretendía respecto a la sentencia de pamplona compartir una reflexión que estoy seguro además que

ante lo que está pasando y cualquier hombre también debería desde luego

señora san josé me parece la verdad me parece bastante grave que

dinamitado esa mesa de diálogo social habiendo expulsado a los sindicatos además

la desfachatez por parte del departamento por parte del gobierno

que son ellos los que se han ido y que tienen que volver y que además usted se reitere en la lealtad a unos acuerdos

de manera bilateral con la patronal y yo creo que usted hoy ha cerrado filas con su gobierno ha cerrado filas con su gobierno y por lo tanto hay una absoluta disonancia entre lo que continuamente dice defender

a decir que defiende en cuanto a la necesidad y a la importancia que ustedes le dan al dialogo social y la práctica real del gobierno respecto al diálogo social y las relaciones laborales

con la patronal ese documento es un documento que afecta a las relaciones laborales y usted no puede decir que cree en la fórmula tripartita cuando firman

de manera bipartita entre ustedes el gobierno y curiosamente pero no casualmente con la patronal porque no lo ha firmado de manera bipartita con los sindicatos ignorando la patronal

y es más que comprensible el cabreo de los sindicatos y creo que

nuevamente en que haya también otros sindicatos que decidieron no participar en esa mesa yo creo que un departamento de trabajo

cuando una parte de los sindicatos no participan en el mismo antes de responsabilizarles de la no participación también debería preguntarse a sí mismo por qué no participan y qué puede hacer que está en sus manos qué hay que modificar para que todas las partes

y puedan sentarse a hablar porque no es cierto que haya sindicatos de ningún tipo que se cierre en banda a cualquier planteamiento porque si no

del pelo que sea hablan negocian y llegan en multitud de ocasiones a acuerdos con sus patrones y por lo tanto a nivel sindical pues eso

de trabajo que crea de verdad en esa fórmula que usted dice creer se tiene lo primero que plantear a sí mismo por qué eso no está funcionando y por qué no estamos todos

ustedes se han cargado una mesa en la que sí había también algunos de los principales sindicatos del país una mesa que dice defender constantemente y que efectivamente está en los papeles

está en los papeles pero no está en la práctica y por eso

en su buena voluntad me preguntaba si usted comparte ese acuerdo porque incluso algún responsable sindical ha dejado caer como que

muy cómoda en eso y si eso es así a mí eso me parece especialmente grave porque desde luego yo

consejero de trabajo y justicia y me encontrase en esa situación hubiera dimitido al minuto uno de conocer la firma de ese acuerdo no sé si a sus espaldas

de la mesa de diálogos que usted dice defender y quiero acabar

que la recuperación de esa mesa no se va a dar pidiéndole a los sindicatos que vuelvan a ella creo que eso es insultarles la recuperación de esa mesa en todo caso se tiene que dar en primer lugar retirando ese acuerdo que han firmado anulando ese acuerdo que han firmado con la patronal y en segundo lugar recuperando la confianza sentándose a hablar con todos los sindicatos

eskerrik asko presidente andrea señor hernández es que no puedo decir otra cosa y créame cuando se lo digo que mi departamento y el conjunto quiere que se restablezcan cuanto antes las reuniones de la mesa de diálogo social por nuestra parte vamos a seguir trabajando en dos direcciones una tratar de reincorporar

y la otra avanzando en el cumplimiento de los compromisos que tenemos adquiridos uno de ellos es la elaboración de la norma que regulará el órgano permanente de la mesa de diálogo social

queremos con ello cumplir con el compromiso del gobierno con los agentes sociales que se recogen en los acuerdos del año dos mil dieciséis desde el departamento de trabajo y justicia cualquiera de sus responsables

entre todos poner en valor el diálogo social me consta que estos sindicatos representativos son conscientes de ello espero sinceramente que las razones que han provocado su marcha

públicamente y en privado que no comparto su decisión de irse de la mesa de diálogo social fundamentalmente por una razón como es que para nosotros no hay ninguna explicación que pueda estar por encima de la necesidad de que nuestra sociedad puede ser con concertación social icono de conexión colectiva euskadik ezin du aurrera egin

eta elkar hartze sozialik gabe euskadi no puede avanzar sin negociación colectiva y sin concertación social euskadi tiene como objetivo el bienestar social y socio laboral euskadi tiene como objetivo el empleo de calidad euskadi tiene como objetivo la mejor formación profesional

salud y seguridad laboral euskadi tiene como objetivo afrontar los retos de la euskadi de la industria cuatro punto cero y otros muchos en definitiva apuntalar el estado de bienestar estoy convencida de que todo esto debemos abordarlo con la implicación de los agentes sociales

para el funcionamiento democrático de nuestra sociedad con su capacidad y obligación de acordar por parte del gobierno reforzando el compromiso de garantizar que se tiene el instrumento adecuado para que haya esa concertación social y este no es otro que la mesa de diálogo social permítame por lo tanto reiterar nuestro llamamiento a comisiones y ugt al diálogo social por reconozco que

de los ausentes permítame que también que no hable por mi parte y la del resto de responsables del departamento de trabajo y justicia

por fracasado el diálogo social espero que se superen las dificultades surgidas y usted ha escuchado hoy aquí al lehendakari primero y a mí ahora y ambos hemos reiterado nuestra inequívoca apuesta por el diálogo social

presidenta y para concluir la sesión de preguntas señora consejera esta pregunta más que

entre interrogantes es como solicitar una opinión no es decir los

han ofrecido una propuesta que ha tenido buena acogida por los grupos parlamentarios y por lo diferentes actores económicos y sociales del país eso

une de alguna manera porque esta iniciativa de la que estamos hablando entronca la economía social con la empresa mercantil de una manera pues clara

la búsqueda de nuevas fórmulas de organización de empresas siempre tiene que ser observada con interés y nosotros así lo hacemos porque lo estamos apoyando no o sea economía social una iniciativa que viene de un foro

económica distinta en relación con el papel de la economía y un acuerdo

los promotores de esta iniciativa pues también trajeron antes una que pretendía una ley de sociedad civil particular de responsabilidad

con participación de trabajadores pero era difícil de articular según dictamen del propio gobierno y finalmente pues tras analizar los textos sobre la participación de los trabajadores en la empresa todos los grupos

sobre el modelo inclusivo participativo vasco de empresa una iniciativa además que también es aceptada por confebask y por otros organizaciones sociales es decir

confebask después de alguna intervenciones parece que se plantea como el malvado de la

absolutamente alejado de la sociedad lo digo todo esto desde luego entre comillas no entendemos que ha tenido también una recepción positiva en relación hemos podido consultarlo con este tipo de iniciativa por eso

preguntamos cómo valora su departamento la viabilidad de la propuesta

señor barrio me solicita una valoración sobre esa viabilidad de esa propuesta de la fundación

quiero comenzar expresando mi valoración positiva del interés social de la iniciativa a la que se refiere esta aseveración tiene relación directa con las dos competencias que tiene el departamento de trabajo y justicia que son la economía social y la responsabilidad social empresarial

que se presentó por parte de todos los grupos parlamentarios en esta cámara y que luego ha sido retirada espero o entiendo que para ser mejorada

incidiendo en los puntos que considero más relevantes en lo referente al punto uno de la parte

inclusivo participativo vasco de empresa para su desarrollo en la presente legislatura estamos de acuerdo

como es la realización de un esfuerzo por la democratización de la economía que permita un mayor nivel de cohesión social atribuyendo a la persona el protagonismo económico esto desde el punto de vista ideológico o programático pero también quiero hacerle algunas puntualizaciones en cuanto a lo que puede ser la plasmación práctica de la proposición respecto al apartado e del punto uno relativa a la política legislativa como usted también

esta propuesta se ha analizado desde el punto de vista jurídico y en dicho análisis se constata que la comunidad autónoma del país vasco no dispone de competencias para legislar

no favorecería la consecución del objetivo que se pretende el contenido del apartado f tiene su acomodo lógico jurídico en el desarrollo

en dicho precepto se posibilita a las administraciones públicas distintas de la estatal y en el ámbito de sus competencias la adopción de medidas que

sin embargo crear un registro de empresas participadas en el que se inscriban aquellas con un porcentaje de participación en el capital superior al límite mínimo que se fije puede resultar contraproducente a la finalidad pretendida de dar seguridad jurídica frente

yo propondría que este punto se concretara en un desarrollo de la actual ley de sociedades laborales y participadas

trabajando conjuntamente con el departamento de desarrollo económico e infraestructuras y con la spri en la elaboración de una orden que complemente la orden de ayudas que publica la spri

entendemos que es perfectamente viable contemplar dichos apartados en el plan propuesto en el punto dos se hace referencia a una competencia que se encuentra en otras administraciones públicas como son las diputaciones forales y sobre la cual prefiero no pronunciarme señor barrio como veo que casi se me ha agotado el tiempo espero que haya respondido a lo que usted me ha formulado eskerrik asko

las posibilidades de trabajo del gobierno vasco en relación con este tema pero

presentamos y retiramos y tendremos que volver a presentar porque hay algunos matices que adecuar

le pedía esa valoración implementar e implantar ese plan de actuación fórmulas normativas registro de empresas participadas recientemente también presupuestariamente algunos recursos necesarios

alguna serie de campañas de sensibilización es decir es un elemento importante y por qué porque se está estableciendo un nuevo modelo un nuevo modelo de empresa es muy interesante lleva funcionando

y ahora pues en este marco de la economía social y en ese sentido ha estado

parece que empieza ahora a tomar valor que cohabita además que cohabita con las empresas de economía social

desde luego espero que fruto de esa reflexión que nos ha hecho se despejen algunas dudas para que podamos seguir estableciendo

bueno simplemente decir que cuando tengamos la iniciativa desde luego la estudiaremos

el parlamento vasco insta a la agencia vasca de cooperación a continuar e incrementar en su caso la colaboración con unrwa el parlamento vasco insta al gobierno del estado a mantener su contribución

en el ejercicio dos mil dieciocho una contribución extraordinaria respondiendo

por medio de la agencia española de cooperación internacional para el desarrollo y establecer un marco de asociación

así como un marco de apoyo presupuestario plurianual eusko legebiltzarrak

hiru el parlamento vasco muestra comprensión con la decepción e indignación de las mujeres

cuatro el parlamento vasco reafirma que todas las instituciones deben actuar en el marco del derecho

y de cualquier otra naturaleza contra las libertades de las mujeres bost eusko legebiltzarrak berretsi egiten du duen konpromisoa aurrerantzean ere lanean jarraitzeko